muchas gracias presidenta buenos días a todas y todos señoras y señores consejeros señor lehendakari traemos a debate porque hemos sido varios grupos los que hemos decidido

el fraude en la contratación pública de comedores escolares la autoridad vasca de la competencia ha emitido recientemente una dura resolución

señala que siete empresas de catering han estado actuando durante años como un cártel repartiéndose lotes y fijando al alza los precios de los concursos para el suministro

del gobierno vasco el escándalo afecta a la mayor contrata del departamento de educación del gobierno vasco la multa impuesta a las empresas afectadas por la autoridad vasca de la competencia la mayor de la historia dieciocho millónes

una cantidad que en todo caso quedaría lejos de los beneficios que estas empresas habrían obtenido

más de doscientos millónes de euros de dinero público el sistema de contratación consistía en que las empresas que querían concurrir tenían que

de las instalaciones a la posibilidad de servir con garantías esos miles de menús diarios se les pedía para hacer esa homologación se convocaba un concurso que curiosamente siempre ganaba la misma empresa el laboratorio no tenía la categoría de ente

en una serie de lotes a partir de ahí concertación de precios y reparto de lotes por parte de las mismas empresas y así durante años sin que ningún gobierno haya movido un dedo para

estas prácticas fraudulentas la autoridad vasca de la competencia denuncia que las prácticas que señala se habrían llevado a cabo durante al menos una década y que no puede garantizar que dichas prácticas contrarias a la competencia no comenzaran antes teniendo en cuenta que el sistema de contratación denunciado

irregularidades los tratos de favor y el quebranto a miles de familias desde entonces frente a las declaraciones de la consejera de educación insistiendo en que las familias no se han visto afectadas la propia autoridad vasca de la competencia señala que

que si ha habido un sobreprecio no haya repercutido en parte en las familias es una evidencia que se ha producido un quebranto millónario a las arcas públicas

todos los ciudadanos y en concreto las familias cuyos hijos acudían a esos centros públicos las mismas empresas se llevaron los mismos contratos durante años y siempre al precio máximo de licitación una empresa privada examina y decide qué empresas pueden competir y presentarse

la misma durante largos años laboratorios araba además ni el técnico del gobierno vasco estaba acreditado ni la empresa tenía acreditación para a las empresas por lo tanto se ha producido un sobrecoste como digo de más de doscientos millónes de euros se ha beneficiado durante años

empresas se ha perjudicado gravemente a las familias de los centros públicos estos hechos fueron denunciados durante años y lo cierto es que el gobierno vasco decidió no mover un dedo con lo cual concluimos que el gobierno vasco los diferentes departamentos de educación de los últimos años son responsables por acción o por omisión estos son los hechos y a partir de ahí parte propositiva que hemos incluido en la moción registrada qué es lo que nosotros pedimos con esta moción lo que pedimos es que este parlamento

daños y perjuicios por los sobreprecios acordados actuando como un auténtico cartel para repartirse el contrato de suministro de los menús escolares que modifique

de tal forma que se evite el fraude y se garantice la calidad de los alimentos suministrados proponemos también respete la decisión de las comunidades escolares para elegir el modelo de servicio de comedor que quieran establecer en su centro facilitándoles las condiciones necesarias

desarrollarlo pedimos también que la multa de dieciocho millónes de euros impuesta por la autoridad vasca de la competencia a las empresas que suministran los menús escolares repercuta directamente en los comedores de los colegios de la red pública mejorando las instalaciones de los mismos y se aumente la dotación

que investigue también a las empresas adjudicatarias del servicio durante la última década para conocer si además de funcionar como un cartel organizado para repartirse el mercado

de delitos esto es lo que nosotros hemos propuesto a través de esa moción el resto de grupos que ha presentado moción y otros grupos que han presentado enmiendas a estas mociones presentan también en nuestra opinión

aportaciones entre ellas evidentemente pedir al gobierno vasco que remita a la fiscalía anticorrupción la resolución de la autoridad vasca de la competencia al reparto concertado de los lotes del servicio de comedores de los colegios públicos todas o casi todas las propuestas que plantean los diferentes grupos en relación a esta cuestión son asumibles creo que por la mayoría de los grupos de este parlamento lo que hace falta ahora es que entre todos

estas reivindicaciones ha existido un fraude monumental durante largos años se ha producido un quebranto millónario en las arcas públicas el gobierno vasco durante largos años prefirió mirar para otro lado no movió

siendo esto así es lógico pensar que los diferentes grupos parlamentarios exigiremos responsabilidades al departamento de educación y al gobierno vasco como digo por no haber impedido este fraude monumental que ha perjudicado a los intereses de la ciudadanía vasca como digo esta es la moción presentada por upyd pero espero que seamos capaces de llegar a un acuerdo en los próximos minutos que pueda salir adelante con el voto mayoritario de los grupos de esta cámara evidentemente pensamos que esto no puede quedar así que este parlamento tiene que estar a la altura de las circunstancias

cometido no solamente tiene que denunciar la inacción de los diferentes gobiernos sino que además tiene que plantear iniciativas proactivas para que esto

y evidentemente remitir el escrito de la autoridad vasca de la competencia a la fiscalía anticorrupción para que pueda analizar los posibles delitos que habrían incurrido las diferentes empresas o el propio o departamentos del gobierno vasco espero por lo tanto como digo que en los próximos minutos lleguemos a un acuerdo transaccional yo todavía no he podido hablar ni conversar con el resto

evidentemente la observaremos con mucha atención para ver si efectivamente ahí están recogidas las principales reivindicaciones de los grupos que espero en todo caso que así sea nada más

muchas gracias señora presidenta señorías se ha dicho ya pero

que podamos repasar exactamente de qué estamos hablando irregularidades que tienen su origen no solo

efectivamente ha hecho un estudio en relación con los últimos diez años sino que efectivamente hemos podido comprobar por los datos que ya son públicos que esto

viene ocurriendo desde mil novecientos noventa y siete irregularidades que tienen su origen en el propio sistema de contratación que estableció el gobierno vasco

escolares de la red pública las mismas empresas se han llevado todos los contratos las mismas durante los últimos dieciocho años y siempre al precio máximo de licitación yo creo que es muy importante que lo podamos repetir sobre todo para que los medios públicos vascos etb que dedica un minutaje muy importante a hablar de las naranjas de valencia y de otros casos rebusca

sería muy importante que etb también se dedique a hablar de los casos bajo sospecha

a uno de los casos más graves que se han destapado en relación con

y que podemos estar hablando de un fraude de más de doscientos millónes de euros

afectar a responsabilidades claras del propio gobierno vasco

durante todos esos años ni los técnicos puestos por el departamento de educación para supervisar el contrato más importante que cada año realiza

ni los técnicos puestos allí para coordinar y supervisar ese contrato ni los responsables políticos del departamento

a pesar de las denuncias a pesar de las denuncias de las empresas y de los propios grupos en este caso

resulta absolutamente atípico e irregular un proceso que

estamos convencidos para facilitar el fraude desde su fase inicial porque se establecieron unos criterios que no son comparables a ningún otro concurso público se estableció un filtro un filtro

casualmente siempre la misma siempre la misma

quién se podía presentar y quién no se podía presentar a ese concurso una empresita alavesa laboratorios araba que decidía qué empresas

que solo podían participar las mismas empresas y casualmente

es el que facilitó que las mismas empresas se llevasen

casualmente ningún técnico del departamento observó que se estaba pagando un treinta por ciento más en cada uno de los lotes año tras año que una ikastola

doscientos menús sacaba un treinta por ciento más barato los precios que el gobierno vasco que contrataba noventa y dos mil menús al día

en el gobierno vasco les parecía lo lógico pagar un treinta treinta y cinco por ciento de sobreprecio en los comedores escolares en unos años en los que efectivamente todos insistíamos en que era necesario revisar las tarifas de comedores que pagaban las familias vascas casualmente

como digo siempre se homologaba a las mismas empresas siempre lo hacía la misma empresa con la connivencia estamos convencidos de los responsables públicos no es posible que durante dieciocho años ocurra esto sin que nadie en el gobierno vasco se dé cuenta

multimillónario estamos hablando de mil y pico millónes de euros de los cuales entre un veinticinco por ciento y un treinta y cinco por ciento de sobreprecio supone que estas empresas llevado doscientos y pico millónes de euros más que no les correspondía y que desde luego se podían haber abaratado las tarifas

es imposible como digo que esto pase sin connivencia

es que el departamento la propia consejera señorías aquí nos vino a reconocer que efectivamente

pnv y el gobierno vasco habían decidido modificar este sistema que permitía el fraude y entonces habían cambiado el sistema lo habían estudiado muy bien y el último concurso finales de dos mil quince

para los próximos cuatro años que esto no va por año no no es para los dos próximos años más dos años de prórroga

se cambia las condiciones para que todo siga igual

parezca que el gobierno vasco ha hecho algo que el departamento ha intervenido pero se modifican unas condiciones para qué para que cambiando la empresa filtro o sea apartamos a como lo explicaba otro día pero lo digo porque para que en etb

lo repito no les importe a ustedes es que se retira a la empresa filtro durante los últimos dieciocho años con la que se han beneficiado estas siete empresas casualmente tres pertenecen a la mismo grupo y resulta que se modifican las condiciones para que

o sea aunque les colocasen a cualquiera de ustedes no ustedes

seguirían dándoles a las mismas siete empresas los concursos porque efectivamente se coloca aenor para que digamos coño con aenor oye pues cómo no nos vamos a fiar de aenor que lo ha puesto aquí de filtro

que efectivamente solo nos conducen a que solo puedan participar estas mismas siete empresas porque claro las exigencias de las condiciones del contrato nos llevan a que solo esas empresas puedan participar y puedan ser homologadas casualmente

el gobierno vasco en un tema tan grave está pendiente de que se cumplan las nuevas condiciones dicen no no vamos a exigir que haya libre competencia libre concurrencia oiga en cada lote

vamos a exigir que participen al menos dos empresas distintas oiga pues tenemos que en cinco lotes participan dos empresas distintas pero pertenecen al mismo grupo

concurriendo con dos nombres diferentes y eso se permite para qué para que una vez que hemos repartido los diez lotes en dieciocho lotes y bueno parezca que hemos cambiado el sistema qué ha pasado en dos mil quince con la nueva modificación

que las mismas siete empresas se han llevado los lotes y se han llevado los lotes

en los más importantes se sigue cargando el máximo de licitación el treinta por ciento sobreprecio en otros para disimular no y qué ha pasado en los lotes en los que no había libre concurrencia donde solo participaba una empresa

la que lo venía haciendo hasta ahora que era una de las empresas multadas

han decidido que no se lo lleve nadie para que lo siga haciendo

que es la que se llevaba la parte del león de todo este sistema y además cómo lo va a seguir haciendo pues al precio máximo claro con el sobreprecio del treinta por ciento luego

hemos conseguido un pequeño ahorro de siete millónes pero vamos a seguir dándoles a esas empresas otros veinte millónes de beneficio

las mismas empresas multadas las mismas empresas que el tribunal que la autoridad vasca de la competencia ha dicho que nos estaban tomando el pelo han dicho que estaban cometiendo un fraude han dicho que había una concertación clara para aprovecharse y beneficiarse de una mayor contrata pública del departamento de educación

que sean las mismas empresas la que se vuelva a llevar los lotes y que se lo lleven además

al precio máximo esto nos lleva a pensar señorías señora presidenta que el departamento de educación no tiene ningún interés para resolver esta situación por eso nos hemos visto obligados a presentar

moción como consecuencia de la interpelación que presentamos a la consejera con qué ánimo con el ánimo de que se impugne el último concurso porque nos parece que es un engaño absoluto

que se pidan daños y perjuicios a las empresas que se demuestre que el gobierno vasco no está conchabado en este fraude que puede ser

el mayor fraude cometido a las arcas públicas en los últimos años esto se puede hablar sí se puede hablar señora presidenta de corrupción y nosotros pensamos no solo

de una manera verdadera hay que modificar el concurso hay que impugnar el concurso anterior y además hay que dedicar el dinero que se han llevado crudo estas empresas a abaratar las tarifas de los comedores
de las familias vascas nada más muchas gracias eskerrik asko oyarzabal jauna

gracias presidenta yo no voy a hacer un panegírico de pedro sánchez porquecreo que eso toca en otro foro distinto de este

de los centros públicos se hayan podido concertar para repartirse el mercado y fijar los precios según dice la autoridad vasca de la competencia creo que es algo

algo que debiéramos hacer independientemente de cuál sea el desenlace del recurso anunciado por las ocho empresas investigadas contra la sanción que se les ha impuesto

pone de manifiesto que conductas colusorias que se han ido conociendo en otros sectores de la economía se pueden producir también de hecho parece que se han producido

menos sospechas ya sabemos que cuando empresas rivales se ponen de acuerdo es para reducir la competencia y aumentar sus beneficios perjudicando a los consumidores esto es algo que ha sucedido con los concesionarios de coches o los fabricantes de papel

el año pasado la comisión nacional de los mercados y la competencia desmanteló catorce cárteles

por no hablar de los expedientes multimillónarios incoados por la comisión europea en el caso que nos ocupa se interpela directamente al gobierno porque afecta a un servicio que presta al gobierno directamente y en un área muy sensible

de los centros públicos por lo tanto no se puede sacudir el asunto como si fuera simplemente polvo del camino sí hay que precisar sin embargo que en su investigación la autoridad vasca de la competencia no ha apreciado y lo dice

por parte de la administración en las conductas penalizadas se han cumplido las normas de contratación pero del expediente abierto se desprende que estas normas

porque en sus bases buscan garantizar muchas cosas pero desde luego no el principio de la competencia y esto es algo que hay que tener en cuenta a partir de ahora

existen también mercados cautivos a los que hay que prestar atención no solo desde el punto de vista de la legalidad

sino también desde la perspectiva de la competencia porque su restricción no solo perjudica a las empresas que puedan verse excluidas por un reparto del mercado sino también a los que pagan por ese servicio un precio no fijado de forma competitiva en esta situación creada podemos actuar de dos formas con efectismo o con responsabilidad y nosotros vamos a tomar el segundo camino buscando soluciones a los problemas que se han puesto de manifiesto y garantizando en todo caso el mejor servicio a los escolares que utilizan el servicio de comedores de gestión directa

creemos que las propuestas contenidas en las enmiendas a la totalidad que hemos presentado a las tres mociones que en el fondo son una dan una repuesta bastante completa a las cuestiones que este episodio ha puesto sobre la mesa y asimismo queremos aquí felicitarnos por haber sido capaces de llegar a una enmienda de transacción con el grupo nacionalista

se insta al gobierno a que envíe a la fiscalía la resolución dictada por la autoridad vasca de la competencia para que analice si en las conductas que este órgano considera probadas y que penaliza en su ámbito de actuación hay además responsabilidades punibles de otro tipo

la autoridad vasca de la competencia ha considerado que las ocho empresas adjudicatarias del servicio de comedores han vulnerado las reglas de la libre competencia empresarial al repartirse el mercado sin pujar precios para hacerse con lotes a concurso

en otras conductas ilícitas eso es lo que pedimos que valore la fiscalía que es quien tiene capacidad y criterio para hacerlo y que además actúe en consecuencia otro de los aspectos que ha suscitado la investigación de la autoridad vasca de la competencia

habría causado al no competir realmente para hacerse con el servicio la propia autoridad ha señalado

que marcaba el departamento de educación se encuentran en la media de lo que es habitual en los comedores escolares de las demás comunidades autónomas pero también indica que la mayor competencia en precios registrada en este curso escolar

ha supuesto un ahorro de siete millónes de euros respecto al curso anterior

lo cubren en un sesenta y cinco por ciento las familias y en el treinta y cinco por ciento restante el departamento de educación que también da becas de comedor a los alumnos con menos recursos en consecuencia parece razonable también solicitar al gobierno

un daño patrimonial y si la conclusión fuera positiva que sus servicios jurídicos acudan a los tribunales de justicia para intentar resarcir a las arcas públicas

del servicio que se habría producido para mayor beneficio de las empresas adjudicatarias en el tercer punto

en concreto la conveniencia de introducir en las condiciones de los contratos cláusulas destinadas específicamente a garantizar la competencia entre las empresas concurrentes

y también la posibilidad que habrá que estudiar de aplicar otras formas distintas de gestión de los comedores escolares la confederación de padres y madres de la escuela pública lo ha recordado el señor lazarobaster ha reclamado la puesta en marcha de un programa piloto

en cuatro centros como se aprobó hace dos años en la comisión de educación en cualquier caso bildu parece que se inclina en su moción de hoy porque cada centro

de analizar todas las propuestas lo razonable es estudiar con las partes implicadas con todas ellas si caben otras formas viables de atender a los comedores

con qué personal e instalaciones a qué coste y con qué controles económico financieros

metamos a los colegios y a los padres en otros problemas mayores pues bien

son quienes se ven más directamente interpelados por la resolución de la autoridad vasca de la competencia en este asunto y por lo tanto no pueden ponerse de perfil como si no fuera con ellos

que ha aparecido bajo su responsabilidad la del departamento están los centros educativos y el servicio de comedores y por lo tanto su responsabilidad es corregir

y mejorarlo en todo lo posible eso es lo que los socialistas pretendemos con las iniciativas que proponemos y que finalmente hemos firmado en esta enmienda transaccional
con el grupo nacionalista y con el grupo de euskal herria bildu muchas gracias eskerrik asko pastor jauna

aldatu du el modelo actualmente vigente después de la modificación

cuando la propia empresa denunciante no solo no ha impugnado nada del mismo sino que ha participado en la licitación

miente cuando dice que no han podido presentar más que las mismas

un caso desde la nada implicarle en cuestiones que no tienen

en cuanto a la concurrencia de empresas del mismo grupo si se hubieran trabajado un poco el tema en vez de intentar

hubieran visto que está avalado por sentencias del propio tribunal supremo si quieren ya se las daré en su momento en cuanto al porqué de los pliegos

la exigencia de calidad salubridad etcétera y es por lo que se hacen los pliegos de condiciones de ese modo pliegos que por otra parte nadie ha impugnado el propio señor arratibel

sino contra el modo de hacerla por lo tanto no parece que haya motivos para rebajar esas exigencias como ya se ha dicho también ahora la homologación la hace la mesa central de contratación y aenor

y de ahí el punto tres de la enmienda de transacción en la que no me voy a extender porque ya anteriores portavoces lo han hecho

en cuanto a la derogación de los contratos vigentes supongo que quiere decir resolución solo puede realizarse siguiendo la legalidad vigente

pero estamos abiertos a que nos indique los fundamentos jurídicos y la normativa aplicable que pueda propiciar dicha decisión

en cuanto a la solicitud de daños y perjuicios ahí está el acuerdo de transacción que hemos firmado con el grupo socialista en el punto dos diruaren erabilera en cuanto al destino del dinero recaudado tengo que recordar a los grupos que siempre han defendido aquí la idea de que para que el servicio sea sostenible en el tiempo ha de tender a la autofinanciación

por lo que queda claro que las cuotas establecidas a las familias no dependen en absoluto del precio de los contratos

otra serie de servicios distintos a la propia comida como el acompañamiento o la vigilancia de los centros escolares

además el dinero destinado a los comedores a día de hoy es suficiente y por lo tanto no tiene sentido

por la sanción cuando los principios de la hacienda pública dicen que todos los ingresos financian todos los gastos

erantzukizun legal eta politikoak en cuanto a depurar las responsabilidades legales y políticas de acuerdo

estamos de acuerdo con el resarcimiento por daños y perjuicios y en cuanto a depurar responsabilidades ahí está

la resolución de la autoridad vasca de la competencia se ponga en conocimiento de la fiscalía pero vamos a profundizar en esta cuestión que es donde han profundizado también los grupos proponentes de las mociones hay que realizar el análisis en dos niveles diferenciados el primero es el relacionado con la práctica colusoria de las empresas

y el segundo el procedimiento de homologación en cuanto al primer nivel se plantea por el señor oyarzabal que es increíble que durante todos estos años de dicha práctica colusoria

hombre yo añadiría que siguiendo este criterio sería igual de increíble que los parlamentarios que han debatido en numerables veces el tema de los comedores escolares en este parlamento

que hemos realizado y que sin exclusión absolutamente todos

funcionaba bien y más en concreto usted señor oyarzabal que es el parlamentario que más años lleva como tal en temas de educación y que ya lo hacía ya estaba en estos menesteres cuando se adoptó el acuerdo y continúa a día de hoy diría más el que usted que fue socio de gobierno tampoco se enteró de nada por lo tanto no parece que la cuestión fuese tan evidente

que siendo un órgano especializado tuvo que emplear la prueba de presunciones en el sentido señalado por el tribunal constitucional tribunal supremo y el tribunal europeo de derechos humanos

se analiza con detenimiento el expediente lo último que se puede deducir es que hubiera una práctica colusoria evidente es justamente lo contrario a evidente

por no haber detectado dichas prácticas y más inaceptable todavía que lo haga usted señor oyarzabal

y es ese burdo intento de focalizar en el actual gobierno

es increíble semejante actuación el actual gobierno se encuentra a su llegada con una denuncia ante la autoridad vasca de la competencia

del gobierno vasco competente en materia política económica y defensa de la competencia que como se ve y esto sí que es evidente actúa abriendo el expediente seis barra dos mil trece y cuya resolución es la que ha originado todo lo que hoy estamos debatiendo aquí por lo tanto cómo se puede achacar al gobierno actual

si ya ha actuado al instante mediante el órgano competente establecido al efecto

vayamos a la segunda parte el proceso de homologación

cuando el técnico que ustedes citan está en el departamento desde el año dos mil diez

se dice que es un proceso pensado desde el principio para el fraude en su fase inicial la validación de empresas es aquí donde

y concluye que ha habido un trato de favor y complicidad por parte del gobierno pues bien en primer lugar debo decir que el procedimiento de homologación es un procedimiento legalmente establecido

dijo yo no me estoy quejando de que haya un proceso de auditoría no no

esa auditoría de las personas que lo hacen es lo que yo vengo a denunciar y no vengo a denunciar nada más de aquí

de los distintos gobiernos esta cuestión sin embargo está resuelta en vía judicial ya que comercial aibak recurrió en la vía judicial todas las cuestiones citadas

el acuerdo al respecto del órgano administrativo de recursos contractuales de la comunidad autónoma que rechazó sus pretensiones

sala de lo contencioso administrativo número quinientos ochenta y dos barra dos mil doce de ordinario

de la empresa del señor arratibel quedando claro que la denegación de la homologación

dicha empresa la sentencia responde a cada una de las pretensiones y dice entre otras cosas que las alegaciones del recurrente pueden calificarse

porque además de no ajustarse al modus operandi contenido del informe del equipo auditor remite

sin trascendencia a los fundamentos y resultado de la valoración y además sanciona en costas a la demandante como se puede comprobar el tribunal de justicia muestra con absoluta claridad la limpieza de la actuación

sin embargo usted señor oyarzabal sin ningún argumento distinto a los utilizados en su demanda por el señor arratibel y yendo infinitamente más lejos que el propio empresario en sus valoraciones enmienda la plana al tribunal superior de justicia y acusa a los distintos gobiernos como cómplices en la actuación ilícita a las empresas pero si esto fuera poco usted con una obsesión inexplicable trata de poner el foco en la responsabilidad

que si no hubiera quedado ya absolutamente clara la cuestión por la citada sentencia judicial vista la sucesión temporal de los hechos el actual gobierno no tiene absolutamente nada que ver con el procedimiento

ya que este se produjo en el año dos mil once cuando usted señor oyarzabal era socio imprescindible del gobierno vasco que no era del pnv

de aquel proceso sin embargo hay una cuestión que me preocupa profundamente

en temas de educación como tal y que era socio imprescindible del gobierno vasco en el año dos mil diez en el pleno celebrado el veinticinco de octubre de dicho año

sobre la gestión de comedores decía usted señor oyarzabal seguramente es necesario revisar esas condiciones de licitación usted el único que dijo estas cosas

con los parámetros que ya en este momento se consideran que tenemos que perseguir en la escuela vasca estas palabras demuestran que usted señor oyarzabal conocía perfectamente las condiciones de acceso y homologación

en este ámbito se une su condición de socio imprescindible del gobierno y plantea la posibilidad de modificar dichas condiciones voy terminando sin embargo cuando al año siguiente se procede a la licitación del contrato marco

no solo no plantea nada en este sentido sino que avala al gobierno estoy convencido

fue porque no había ningún problema de prácticas ilegales o corruptas tal y como confirmó después el tribunal superior

quiero que me diga y si no es así si estoy equivocado quiero que me explique los motivos para no haber planteado las modificaciones

cualquier actuación del gobierno quedo a la espera de su respuesta que espero que sea

presidenta parece ser que efectivamente el responsable de este fraude monumental de este quebranto millónario a las arcas públicas

oyarzabal no lo es ni el actual gobierno ni los gobiernos anteriores ni los actuales responsables de educación y los anteriores

el partido nacionalista vasco ni siquiera él mismo evidentemente sino que el responsable es el señor oyarzabal nunca es responsable de nada el partido nacionalista vasco este es el resumen de lo que ha planteado el señor arieta que viene planteando básicamente lo mismo durante largos años el partido nacionalista

no es responsable nunca absolutamente de nada ni por acción ni por omisión y esto es otra vez en fin no asumir las responsabilidades de cada uno y tratar de vendernos la idea de que los responsables somos los demás aquí se ha cometido un fraude

aquí ha habido un pacto entre diferentes empresas aquí ha habido un quebranto millónario a las arcas públicas aquí ha habido miles de familias que han sido perjudicadas por un determinado

llevar a cabo estos concursos públicos y resulta que los diferentes gobiernos los diferentes departamentos no son responsables absolutamente de nada

o incluso por haber sido quizás también colaborador necesario esto es un hecho evidente y por lo tanto en fin creo que debería quedar absolutamente claro responsable por lo tanto este gobierno por acción

los gobiernos anteriores y este gobierno en concreto no ha movido un dedo para cambiar en lo esencial el actual modelo y esto es creo que una realidad han llegado a firmar una transaccional los grupos políticos que tienen responsabilidades de algún tipo en este asunto el partido nacionalista vasco eh bildu eusko alkartasuna y el partido socialista de euskadi todos los que han controlado la educación

transaccional y ninguno de estos partidos políticos se ha puesto en contacto ni con upyd ni con el grupo popular

de transacción no ha habido ningún tipo de comunicación a pesar de que hemos sido los dos grupos políticos que hemos traído este asunto al debate y somos los grupos políticos que además queremos llegar

se abra la correspondiente investigación política o judicial en relación a este asunto en concreto una investigación política para saber quiénes han sido los responsables de este quebranto y de este fraude pero en fin esa es la transaccional que ustedes han firmado y viéndola pues evidentemente podemos estar de acuerdo

en el primero de ellos donde se propone instar al gobierno vasco a que ponga en conocimiento de la fiscalía la resolución

vasca de la competencia sin embargo en esta transaccional no se insta al gobierno ni a modificar el modelo que ha permitido el fraude durante años ni a impugnar el concurso anterior ni a que la multa de dieciocho millónes de euros repercuta directamente en los comedores de los colegios de la red pública ciertamente no que no ha habido es siquiera un diálogo con los grupos proponentes

en esa transaccional no ha habido ningún tipo de diálogo ningún tipo de negociación y finalmente esas reivindicaciones planteadas por el grupo popular y por upyd no han sido incluidas en esa transaccional que a nosotros nos parece se queda corta más allá de que lo que se plantee excepcionalmente en el primer punto lo compartamos y nos parezca

en fin ya digo aquí se ha producido un fraude ha habido una concertación de precios por diferentes empresas ha habido un reparto de lotes por las mismas empresas ha habido un quebranto evidente de dinero público miles de familias han sido perjudicadas y evidentemente alguien

ha sido responsable de que todo esto haya podido ocurrir durante largos años

a ese responsable a ese responsable político para que evidentemente

que quepan en esta cuestión en nuestra opinión en mi opinión el responsable

de este gobierno y de los gobiernos anteriores por no haber controlado como se debía este asunto por haber permitido que durante largos años hubiera habido un fraude y por haber permitido

a las arcas públicas nosotros por lo tanto estamos dispuestos a votar de manera favorable especialmente del punto uno de la transaccional que ustedes han firmado pero

votaremos a favor de ella y votaremos también a favor de la moción planteada por el grupo popular

a los demás dejen de echar la culpa de todo a los demás asuman también su responsabilidad ustedes han gobernado durante largos años

no solo es que no hayan querido hablar con los grupos que hemos denunciado este caso

al frente del departamento de educación y sinceramente

de mamporrero para sacudirnos nos damos cuenta claramente de que ustedes no tienen la más mínima voluntad

el discurso que ha hecho usted de abogado defensor de los defraudadores aquí hoy en relación con este caso

de conocer exactamente lo que pasó usted ha venido aquí a defender que todo estuvo bien hubo una limpieza absoluta en todo este proceso y bueno al parecer como han dicho el otro día la aquí hubo unas empresas que se aprovecharon

para qué estaban los técnicos y los responsables del departamento la mesa de contratación

que estemos en el dos mil dieciséis y yo en el dos mil diez como usted ha dicho aquí ya dije que había que

en el dos mil diez ya había datos ya empezaba a correr el run run de que aquí estaba pasando algo raro ya eran demasiados años en los que las mismas empresas se llevaban los mismos lotes sin concurrencia sin competencia al precio máximo

nosotros no gobernábamos con los socialistas a ver si se entera de una vez

estábamos en la oposición junto con ustedes no formamos parte del gobierno pero ni siquiera como me insistían algunos socialistas entonces como decían ellos

aquí durante los últimos treinta y cinco años su partido como todo el mundo sabe

quien ha mandado en este país y sigue mandando es su partido luego usted tendrá que responder de lo que le toca hoy que es esta legislatura y a mí controlar al gobierno de esa legislatura oiga por supuesto que son responsables todos los que no hicieron nada a lo largo de todos estos años claro yo aquí

es responsable este gobierno y los anteriores pero lo que a mí más me sorprende es que mientras responsables de los anteriores gobiernos

están queriendo que se aclare la situación seguramente tendrá la responsabilidad de haber dejado hacer

que siguiesen haciendo las cosas como se venían haciendo seguramente su responsabilidad es haber dejado hacer

a sabiendas de que ya hay denuncias que traiga usted el nombre

que ha fallecido que vino aquí a denunciarlo con un cáncer galopante

le traiga a colación diciendo que yo miento cuando tenemos los papeles aquí

para que se lo sigan llevando crudo los mismos oiga y me dice que han participado otras empresas por qué porque a la empresa del señor arratibel que es la denunciante y para que todo parezca ya razonable además de las siete empresas que han sido condenadas por la autoridad de la competencia

justo la del señor arratible en uno de los lotes de los dieciocho lotes en uno

va a concurrir al lote más pequeño resulta que auzolagun una de las empresas más gordas y más beneficiadas por este contrato

auzolagun hace una oferta a la baja del veinticinco por ciento luego tampoco

entrar en ese lote pequeño se lo volvió a llevar

y casualmente en el único lote donde había una empresa que no era de ese grupito

en el precio ahora el resto de los lotes a precio máximo

las condiciones que pone el gobierno vasco para clasificar la situación es que

tiene que decir a qué lote va a participar luego las empresas que estaban

sabían que la competidora solo participaba en ese lote casualmente en ese lote

ustedes nos están tomando el pelo ustedes quieren salir del paso con esta enmienda en la que dicen que bueno que lo estudien los servicios jurídicos oiga si ya les hemos escuchado a ustedes ustedes son los abogados defensores de estas empresas

de sus servicios jurídicos desde luego no nos fiamos nada porque claro si tenemos que hacer nosotros aquí de controladores

nosotros creemos que ustedes no están aquí por la labor si no impugnan ese contrato si no modifican las condiciones

lo que les han negado siempre que cada ikastola haga lo que le dé la gana con los comedores a ver si con ello se callan no el problema no es que cada ikastola haga lo que le dé la gana el problema es que haya un concurso transparente

donde se respete además a las familias que están pagando por el comedor de sus hijos

hay que pedir daños y perjuicios hay que modificar las condiciones y en su enmienda de transacción

estudiarán a ver qué hay que cambiar y eso es con lo que ha caído aquí y con la millónada que se han llevado crudo estas empresas mientras el gobierno vasco miraba para otro lado
esto es una tomadura de pelo exagerado eskerrik asko oyarzabal jauna lazarobaster jauna zurea da hitza

gracias presidenta yo he dicho en la primera intervención y lo mantengo que hemos venido a tratar de encontrar y dar soluciones a un problema que efectivamente hemos conocido y que es importante mire

no se puede venir haciendo apelaciones al diálogo porque diálogo es un concepto que establece que hablen dos ustedes también podrían haberse dirigido perfectamente al grupo socialista para intentar

yo no he recibido ninguna llamada de ninguno de los dos por lo tanto entiendo que no tenían tampoco excesiva voluntad ni intención de hacerlo

se hace una especie de comparación es que la pública resulta que es mucho más cara que la concertada sí claro

y en otras comunidades del resto de españa porque una cosa que dice también la autoridad vasca de la competencia es que los precios estaban y están en la media española es que la pública

están referenciados al convenio de lakua que como ustedes saben es bastante superior al de hostelería que es el nivel salarial que tienen los trabajadores que prestan ese servicio en la red concertada y tienen servicios añadidos como el de acompañamiento que no tiene la red concertada

situaciones que no son homologables que tienen diferentes características en una y en otra y yo entiendo perfectamente su actitud le ha parecido importante sacar este tema a colación y ponerlo en el foco y yo se lo respeto absolutamente

pero es importante también decir que tanto aquel laboratorio pequeñito al que usted hacía referencia

desde el punto de vista técnico que tienen que cumplir las diferentes

empresas que pueden concurrir en el ámbito de euskadi en el ámbito de españa y en el ámbito europeo porque supongo que usted conocerá que esto se publica en el boletín oficial de las comunidades europeas

cualquier multinacional del sector que estuviera interesado

y luego ocurre y es verdad que es una situación que llama la atención son siempre las mismas son siempre las mismas pero establece determinadas condiciones que las pueden cumplir otras muchas

a la situación y otra cosa muy distinta otra cosa muy distinta

las empresas digo como parece que la autoridad vasca de la competencia establece que pueden haber hecho

por eso nosotros décimos que el fiscal investigue si eso es efectivamente así

para repartirse el mercado y alterar los precios

en cualquier caso a nosotros nos interesa y por eso me parece que lo que hemos firmado

en esa actuación ilícita de las empresas nos interesa que si eso es así y ha habido daño patrimonial el gobierno vasco lo reclame la devolución de ese dinero y nos interesa también que se empiece a poner en marcha el estudio de otro modelo de gestión alternativo

que no tiene porque ser el que salga las confederaciones de padres y madres tienen un proyecto piloto y se pueden establecer otros sistemas no sé los que serán

como hace bildu por ese modelo concreto porque tiene también sus dificultades pero que en cualquier caso

a que el gobierno pueda empezar a poner en marcha desde ya mismo una reflexión seria

me parece que es importante y me parece por tanto que los tres puntos que recoge la moción recogen suficientemente la inquietud que se ha generado en este parlamento

señor oyarzabal está bien que reconozca que le hemos calado la limpieza del proceso no la digo yo

no puede obviar los datos objetivos que le he dado y que no ha rebatido ninguno ninguno dice que no se fía de los servicios jurídicos tampoco del fiscal

la resolución de la autoridad vasca de la competencia tiene como uno de los argumentos más importantes para la aplicación de la prueba de presunciones respondiendo a las alegaciones de las empresas en el hecho de que en ningún modo se puede alegar que el condicionado

pueda justificar la práctica colusoria desarrollada por las empresas contratantes ya que

a esto hay que añadir la sentencia que he dicho antes del tribunal superior de justicia del país vasco

pero además es indiscutible la imposibilidad de pedir ningún tipo de responsabilidad al actual gobierno puesto que además de los motivos ya citados y

la sucesión de los hechos en el tiempo es decir las fechas en las que se producen las actuaciones objeto del debate

hacen imposible ninguna imputación puesto que el actual gobierno comienza su mandato con posterioridad a las mismas pero eso lo sabe usted de sobra

de ilegalidades y que no hizo nada y viene ahora a denunciar a este gobierno desde la nada sin ningún tipo de argumento

objetivamente su responsabilidad aunque sea a sabiendas de que está usted mintiendo hoy ha quedado aquí

que usted no busca la verdad en absoluto usted lo que busca es hacer un caso en la mejor tradición fascista a este gobierno

nada mire señor oyarzabal yo entiendo que ustedes están

pero la porquería se puede quitar o limpiando o haciendo lo que hacen ustedes intentando manchar a todos los demás para así no significarse usted está poniendo el ventilador luego ya sé que le duelen también otras cosas como la pérdida del ayuntamiento la diputación de álava etcétera etcétera y está

en absoluto porque es absolutamente inmoral intentar hacer un caso de donde no lo hay le he dado datos objetivos que usted no ha rebatido en ningún momento y que no tiene interés alguno en rebatir prefiere el sistema de lanzar cuatro mensajes de decirle a etb que diga lo que usted está diciendo

pero que no profundice en la realidad de los datos objetivos ese es usted en este momento y es una pena porque yo le tenía bien considerado pero ya su desesperación

que sabía lo que había usted es parlamentario y no hizo nada es realmente increíble que con tal

pueda llegar a decir eso pero bueno usted sabrá lo que está haciendo

y que no me metiese con él pero es que lo del señor maneiro es el puro esperpento mire señor maneiro

usted ha defendido siempre que el sistema era bueno y no entendía el porqué de los debates que venían en este parlamento y ahí están las transcripciones de los plenos cualquier persona puede ir a ellas

si la cuestión funcionaba perfectamente y entonces ahora viene y va y cambia absolutamente al contrario por qué lo hace pues usted no valora en absoluto ninguno de los argumentos que he dado usted se ha subido al carro

porque usted ya dejó muy claro que para usted el nacionalismo es el enemigo a abatir ideológico usted no entiende el parlamentarismo como compañeros de viaje

el bien público y en ocasiones ser rivales

y entonces al enemigo hay que machacarlo con lo que sea no importa que sea mentira

utiliza habitualmente la mentira en ningún momento va a intentar siquiera valorar ningún argumento

y para cargarme el esquema institucional vasco y a partir de ahí todo sirve y todo vale

porque ambos dos lo han dicho con claridad lo de los anteriores gobiernos bien está bien no no pero aquí el que ha estado durante treinta años

y el único responsable es el pnv efectivamente ustedes hoy no han venido aquí a buscar la verdad han venido a intentar como sea crearle un caso insisto al mejor estilo partista a este gobierno y al partido nacionalista

el último viernes y sobre todo

de las cosas que nos contestó el señor lehendakari el señor lehendakari nos pidió que no hiciéramos demagogia

argumento de ello y yo nunca he entendido que poner la realidad de las cosas sobre la mesa porque este no es un tema nuevo sea ni demagogia ni lenguaje del miedo ni nada parecido porque nosotros lo poníamos encima de la mesa no ahora

no solo relacionado con el sistema de pensiones sino con todo

porque nosotros como país vasco llevamos una trayectoria económica de futuro mala

y por lo tanto cuál es el futuro de un país una región una comunidad autónoma como usted quiera llamarlo

y las previsiones del eustat son todavía peores da igual que sean a cinco años a diez

pero esto es poner un dato encima de la mesa

no nos lo inventamos no es para dar miedo todo el mundo sabe que seguimos siendo los mismos dos millónes cien mil habitantes desde hace treinta y cinco años

y que vamos cumpliendo años todo el mundo lo sabe entonces no es un tema de demagogia demagogia puede ser plantear lo contrario

en la disposición transitoria y desde luego sí que está recogido en todas las sentencias del constitucional

y nos decía que las pensiones en el país vasco estarían más seguras y garantizadas

y a mí aquí se me acabó el tiempo en la interpelación pero ahora

cómo se puede gestionar mejor si los ingresos no cubren los gastos qué mejora de gestión es esa

podría entender que si tuviéramos un superávit usted dice no yo voy a gestionar ese superávit y lo voy a gestionar mejor el señor zapatero también tuvo una idea ahí con el superávit

seguras no lo invertimos en bolsa o sea yo sí me acuerdo

de que mejor no jugáramos con las pensiones en la bolsa verdad cómo que la gestión

va a mejorar el déficit oiga por aquí entra por aquí sale ahí no se mejora nada y luego si hablamos de gestión

la noticia de ayer de lanbide que el año pasado se ha gastado más de treinta y cinco millónes de euros

y me está diciendo que con ese tipo de gestión el déficit que tenemos va a mejorar o a empeorar porque esta es la gestión que hacen ustedes y no me voy a fijar porque supongo que el presidente de su partido

cuando dijo que si las pensiones las gestionara el gobierno vasco

no se estila gastar más de lo que se tiene y se actúa con rigor presupuestario parto de la base de que no está diciendo que como gastamos lo que tenemos y el déficit es

vamos a rebajarlas el treinta por ciento para no gastar más de lo que se ingresa

se entiende eso y luego nos dijo que es que nos negamos a la transferencia porque era perjudicial para el país vasco

como argumento es bastante bueno digo yo hace treinta años en el estatuto se preveía una competencia que oiga vistas las cosas

pero sabe usted que ese no es el motivo porque aquí hay una trama y nuestra moción lo que quiere es desvelar esa trama y en la enmienda que han presentado ustedes vuelven a insistir en el gobierno vasco y el partido nacionalista vasco

es que el estatuto no se cumple es que como no se cumple el estatuto tenemos que ir a otro estatuto que supere el que tenemos

lo cual no deja de ser una contradicción porque si el que tenemos no se cumple y vamos a ir a uno que nos dé más capacidades o más competencias

activas de empleo que tardaron treinta y cinco años en venir al país vasco tardaron porque el gobierno vasco y el pnv

y vinieron cuando hubo un cambio de gobierno y nuevo gobierno se decidió a negociar el traspaso

y entonces llegaron y entonces llegaron y con estas otras con las pasivas llegamos treinta y cinco años y cuando ustedes nos presentan su enmienda o la transacción que viene a ser lo mismo

las competencias que nos corresponden con los convenios que nos corresponden

hombre y además como interpretó el tribunal constitucional al que ahora llaman cicatero en una sentencia

años ochenta años ochenta y esto es lo que el señor lehendakari el otro día llamaba

y cuando ustedes plantean en el punto uno de su enmienda y en la transaccional que

lo que plantean no están planteando perdón

a instancia suya a instancia suya pero el punto dos cuando nos dicen

pues de todo esto que citan ustedes en el estatuto no está recogido nada no está recogido nada

y por lo tanto aquí se viene a hacer una apariencia de que ustedes vienen a pedir que se cumpla el estatuto

incluso la contabilización presupuestaria y autónoma del resultante económico de las citadas operaciones de la seguridad social

pues ustedes me explicaran exactamente qué es es más

esto como proposición de ley con el informe de los servicios jurídicos de la cámara el mismo que sirvió para

a la constitución y al estatuto para quedar patente la imposibilidad de una plenitud legislativa

y en especial en lo referente a su régimen económico máxime teniendo en cuenta el especial énfasis que hace la ilp en la ordenación y gestión tanto de los ingresos como de los gastos

tanto la constitución como el estatuto entonces

que si el estatuto es mercancía averiada oiga es que no nos gusta el estatuto pero no digan que se incumple el estatuto

o si ustedes hubieran querido las políticas fuimos la última comunidad en recibir las políticas activas de empleo diez años más tarde que la última

y todo porque el partido nacionalista vasco y sus gobiernos se negaban a recibirlos y al final a ver si lo que va a ocurrir aquí es que claro

y si uno no quiere llegar a un acuerdo pues va a incrementando lo que pide verdad con lo cual le impide al otro llegar a un acuerdo porque tampoco el otro puede llegar a un acuerdo que sea anticonstitucional verdad entonces

hoy el partido nacionalista vasco que rebasa el estatuto por arriba y por abajo y lo rebaja todo

ustedes no pueden plantear que es que no se nos dan las competencias que nos corresponden o que se incumple el estatuto es que lo están incumpliendo ustedes es que lo incumplen ustedes

y luego ya sin entrar en el hombre su propuesta del sistema propio que por supuesto saben que no es que sea ilegal y antiestatutario sino que además es un desastre es un desastre el

que en el estado por lo tanto tenemos una previsión mejor oiga aquí tenemos el ratio de los peores de toda españa el ratio de los peores de toda españa

como yo y además se publicó el otro día en la prensa no se lo voy a leer porque lo sabe usted perfectamente el otro día el problema de las pensiones en españa claro que es

las pensiones evidentemente siguen subiendo y eso es un problema ese problema cuándo se soluciona cuando se van tomando medidas se acaba con la crisis y se incorpora más gente al mercado laboral

pero nuestro problema aquí venía de cinco años antes con pleno empleo y se lo dije el otro día con pleno empleo éramos deficitarios

como le dije el otro día los pensionistas vascos que han decidido que se van

porque esos se computan como que lo perciben en esa comunidad autónoma y no en esta

los locales etcétera y sin contabilizar las incapacidades temporales

muy bien ahora estamos en tasas de paro que no teníamos hace diez años pero hace diez años teníamos cinco por ciento que prácticamente es cero

y ya éramos deficitarios nuestro problema no es ese nuestro problema es que aquí no se crean nuevos puestos de trabajo que generen más oportunidades a más gente y que seamos más trabajando

no los mismos más viejos ese es nuestro problema que no es tanto en españa en españa la población ha crecido más de diez millónes de habitantes

nosotros cero y por lo tanto cualquier sistema propio

y cuando me decía usted hay que aplicar el concierto económico y una de sus ideas

es complementarlo vía impuestos entonces le diré que nos vayamos preparando porque claro

el concierto económico nosotros recaudamos los impuestos ahora si hay que complementar las pensiones con la recaudación de los impuestos

este año pasado con un presupuesto que tienen ustedes de once mil millónes de euros

un veinticinco por ciento del presupuesto el otro día le pedí que me lo explicara y se lo vuelvo a pedir hoy de dónde van a sacar de qué impuestos

solo para compensar el déficit del pasado porque es que el de este se incrementará en otros trescientos o cuatrocientos millónes y el año que viene porque esta es

de verdad con impuestos ahora bien si en el pacto de toledo en el que también están ustedes

este gobierno se tendrá que ajustar el presupuesto para compensar con nuestros impuestos esas pensiones

y después de todas las medidas para evitar

no las cumplimos no se ha cumplido ninguna de las previsiones que se hicieron cuando se hizo la reforma fiscal ninguna de ellas y yo por lo tanto lo que sí quiero hacer hoy es

que han firmado ustedes con bildu denunciar la política del pnv ustedes denuncian

porque aparentan querer cumplir el estatuto y de lo que se encargan y quieren es

hacer trampas jugando al solitario pero hay cosas peores por ejemplo hacer trampa con las pensiones con el colchón de seguridad que las sociedades avanzadas

unos recursos suficientes al finalizar su vida laboral

es que algunos están haciendo trampa y siento señalarlo esta moción que debatimos hoy tiene un origen una causa el documento que el pnv aprobó

un sistema propio de la seguridad social y pensiones para euskadi y nafarroa y propio para aclarar los términos significa separado segregado al margen del sistema común que tenemos

y tiene un autor el grupo popular la representación vasca de un partido que desde el gobierno central y desde la mayoría absoluta en las cortes ha dado el mayor tajo conocido a nuestro sistema de seguridad social porque la ley

no fue una reforma de las pensiones sino una auténtica contrarreforma un recorte ideológico de necesidad económica y avalado por unos supuestos expertos que hemos denunciado desde este parlamento en al menos tres ocasiones en lo que llevamos de legislatura de modo que aquí estamos entre un pp que quiere presentarse como el paladín del sistema público común

en dicha ley y después de haber dejado temblando el fondo de reserva y entre un pnv que también dice defenderlo

pero a su manera y que ahora nos ha desvelado cuál es su aspiración no intentar mejorar la gestión que está internacionalmente reconocida como muy eficiente sino tener un sistema de seguridad social particular un sistema que ya no sería exclusivamente público y universal

el pnv en su asamblea pero lo que eso significa es que solo podría garantizar una jubilación digna a quienes tengan un empleo de alta calidad y un salario que les permita un elevado ahorro para pagarse un fondo de pensiones privado

y el empleo y en un futuro que se presenta incierto y precario va a ser

una parte considerable de su salario para aportar a una epsv

cuánto va a poder destinar un joven trabajador o trabajadora a su plan de pensiones privado

hemos querido reiterar dos cuestiones que nos parecen fundamentales y de principio dos puntos que han tenido además un amplio respaldo en pronunciamientos anteriores en este parlamento somos coherentes lo primero volver a recalcar la apuesta

universal que garantice la dignidad de las personas

ya sabemos que este sistema está sometido a presiones de todo tipo y que los efectos de la crisis unidos

tienen efectos considerables sobre la sostenibilidad financiera pues habrá que buscar soluciones y adaptaciones pero con un objetivo de mantenerlo

y mediante el acuerdo con los agentes sociales y los partidos políticos no de forma unilateral señores del pp y en segundo lugar volvemos a instar

con seriedad y con lealtad en la negociación del traspaso a euskadi de la gestión del régimen económico de la seguridad social en los términos estrictos

porque no sé si habrá habido mucha o poca voluntad por parte de los sucesivos gobiernos centrales

que los gobiernos del pnv tampoco han facilitado mucho las cosas intentando imponer una interpretación de las previsiones estatutarias que tienen poco que ver con lo que dice realmente el estatuto porque la disposición adicional quinta

en plural y con minúscula y precisa que se garantizará el carácter unitario y el principio de solidaridad del sistema no dice que se hará

y con mayúscula con lo que ello implica porque entre otras cuestiones estamos hablando de cotizaciones de trabajadores y empresas

que es lo que regula el concierto por mucho que se empeñe el pnv en esta materia

un incumplimiento del estatuto por parte de la administración central sino un desacuerdo interpretativo en el que no tiene razón

retrasó durante muchos años la transferencia de las políticas activas de empleo les ha venido bien para denunciar que el estatuto está incumplido sin embargo a la vista del último salto que ha dado el pnv tengo que reconocer que hay algo que nos hemos perdido en los últimos meses

el lehendakari nos dijo el día diecinueve que para su gobierno la transferencia de la gestión del régimen económico de la seguridad social es irrenunciable y que debe abordarse según el estatuto estamos de acuerdo pero claro también empleó sistema propio de seguridad social y no es lo mismo gestionar el régimen económico de acuerdo con la legislación común que tener un sistema propio de seguridad social que es lo que plantea su partido aceptará el lehendakari que afirmar

pero que lo que se desea de verdad es crear una seguridad social al margen de lo que tenemos en españa no es la mejor entrada para negociar lo primero tanto es así

de si el partido en el gobierno quiere realmente asumir la gestión del régimen económico de la seguridad social

cabe sospechar que lo que pretende con esta actitud es más bien lo contrario impedir un acuerdo ajustado al texto estatutario para poder seguir utilizando la excusa

como palanca para su desbordamiento pero si es así no engañen a los ciudadanos

el gobierno puede y va a contar siempre con la colaboración de los socialistas si es para hacer planteamientos y

para el conjunto de la sociedad vasca y para los pensionistas de hoy y de españa pues va a ser que no ahí

defiendo la enmienda transaccional que hemos firmado entre el partido socialista y el partido popular porque viene todo lo que nosotros recogíamos prácticamente en la enmienda a la totalidad que habíamos presentado porque por un lado reitera su defensa

mediante los cuales la comunidad autónoma su mala gestión del régimen económico de la seguridad social

solidaridad y carácter unitario de la caja no entiendo recogiendo todos los puntos que

el grupo upyd no ha firmado al final la enmienda transaccional porque nada de lo que recoge su enmienda es diferente

es una incongruencia pero bueno yo le respeto al señor maneiro

sumarnos a la enmienda transaccional que se ha firmado por el grupo nacionalista vasco y por el grupo eh bildu que hoy se va a aprobar aquí porque no es lo que recoge claramente el estatuto

en la misma también hace referencia a la necesidad de contabilización y presupuestación autónoma del resultado económico de las operaciones referentes al régimen a las cuotas de la seguridad social altas bajas del sistema etcétera

contabilización en cuanto a cifras de altas bajas cuotas etcétera a nivel nacional para eso no se necesita

pero si lo que se refiere aquí presupuestariamente autónomas pues ya estamos hablando de una inclusión entre los presupuestos de la comunidad autónoma diferentes dedicados a esta materia con los cuales no estamos de acuerdo y lo he puesto de manifiesto y en la última enmienda transaccional no recoge la expresión que recogía en su primera enmienda el partido nacionalista vasco y el grupo eh bildu donde hablaban de un sistema propio literal sistema propio de protección social de euskadi sino que ahora pone

en mantenimiento en euskadi de un sistema de protección social público que viene a ser lo mismo pero dicho de otraforma entonces no estamos de acuerdo con eso y por tanto

el grupo socialista ha defendido en estas materias el respeto y la defensa del sistema público de pensiones y luego que se lleven a cabo los convenios necesarios

para que se puedan asumir aquí la gestión del régimen económico del sistema de

sí gracias presidenta el grupo popular nos proponía inicialmente instar al gobierno vasco a negociar el traspaso de

aun reconociendo que el partido popular pretendía destapar las mentiras del partido nacionalista vasco nosotros no creemos que debamos instar al gobierno vasco a negociar nada en relación a esta cuestión creo que lo que debemos hacer es

al gobierno de españa a impedir la ruptura de la caja única de la seguridad social y por tanto mantener

como mejor forma de garantizar la mayor fortaleza posible y la estabilidad del sistema de pensiones la igualdad del conjunto de los ciudadanos españoles así como en este caso el propio bienestar y los propios intereses de los ciudadanos vascos es decir

y el actual sistema único porque es el que más nos interesa a todos porque es el que está en peligro y porque solicitar la transferencia de la gestión económica de la seguridad social no tendría realmente ninguna repercusión relevante para la ciudadanía vasca y por lo tanto más allá de lo que diga la constitución y el propio estatuto

nuestras pensiones iban a ser mejores o el sistema iba a ser mejor gestionado

engañar a la ciudadanía vasca y por eso nos parece más apropiada nuestra enmienda que lo que propone es instar directamente al gobierno de españa a mantener el sistema

única porque además el asunto más relevante es que el partido nacionalista vasco nos amenazó nos amenaza y nos seguirá amenazando en el futuro

en fases sucesivas primero el traspaso de la gestión económica del sistema y luego la creación de un sistema propio y ante esta pretensión del partido nacionalista vasco

los no nacionalistas es que no estamos de acuerdo con esta pretensión porque perjudicaría gravemente los intereses de los propios ciudadanos vascos como perfectamente sabe el partido nacionalista vasco la propuesta que el partido nacionalista vasco ha presentado públicamente recientemente

no solo anticonstitucional sino directamente una mamarrachada impresentable carente de rigor llena de mitos y vacía de datos que demuestra si no es el desconocimiento que sobre la materia tiene el nacionalismo en general y el partido nacionalista muy en particular

sería que en fin lo que pretende es engañar y confundir al conjunto de la sociedad vasca en un supuesto de seguridad social vasca

en más de un quince por ciento por lo que para mantener las pensiones en equilibrio con la recaudación habría que rebajar todas las prestaciones en ese quince por ciento se garantizarían así las pensiones

garantizar las pensiones pero rebajadas en un alto porcentaje

lo que se debería hacer es financiar vía impuestos bien cuáles son los recortes que plantea el gobierno vasco

para poder financiar esas pensiones nunca lo ha explicado ni lo ha explicitado porque sabe perfectamente que esto supondría una quiebra del propio sistema y un grave perjuicio a los intereses de los pensionistas vascos por otro lado el imaginario nacionalista siempre introduce una cuestión en este debate el mito ridículo de que

y esa mejor gestión supondría un mayor ingreso que permitiría mantener las pensiones vascas en el actual nivel de prestaciones sin necesidad de incrementar las cotizaciones ni rebajar las pensiones otra mentira lo cierto es que la gestión de la seguridad social es de un contenido técnico altamente especializado

por personal perfectamente cualificado para dicha gestión

en la misma y con unos niveles de eficiencia y de eficacia inigualados por ninguna administración pública española

hay que señalar que en la actualidad el gobierno vasco no tiene ni un solo departamento ni un solo

que se acerque ni de lejos a los niveles de calidad de la gestión de la seguridad social

organismo digamos que gestiona cuestiones en alguna manera parecida a la seguridad social es lanbide y ya sabemos cuál ha sido la gestión de lanbide durante los últimos años un desastre absoluto y precisamente los problemas lanbide son consecuencia no de sus propios trabajadores sino de las malas decisiones políticas tomadas por este gobierno por lo tanto se demuestra esto de que es falso esto de que aquí las cosas las gestionamos mejor o el partido nacionalista vasco gestiona mejor

a este asunto queda demostrado que esto es perfectamente falso el lehendakari decía recientemente que la ciudadanía vasca tiene interiorizado que sus pensiones van a estar más seguras

lo tiene interiorizado porque esto mismo es lo que ha sucedido con la salud la educación o la protección social

tiene menos porque un sistema es más viable cuantas más personas coticen y recuerdo decía en euskadi cotizan sesenta y cuatro de cada cien y en españa cincuenta y siete

esto es mentir a la sociedad efectivamente euskadi a día de hoy es deficitaria y por lo tanto lanzar este tipo de mensajes es engañar y engañar a sabiendas porque el partido nacionalista vasco sabe que lo que propone es absolutamente inviable euskadi es deficitaria desde hace años en relación a las pensiones euskadi era deficitaria incluso cuando tenía pleno empleo euskadi es deficitaria en más de dos mil quinientos millónes de euros y como el propio señor damborenea ha explicado aquí contar los pensionistas que exportamos sin contar los gastos de funcionamiento y sin contar las incapacidades es de los territorios que peor ratio cotizantes beneficiarios tiene y esto lo sabe también el gobierno vasco y esto lo sabe el partido nacionalista vasco y no explicarlo así a la ciudadanía vasca

a esa sociedad vasca hay que mantener por lo tanto el sistema de caja única cuáles son las bondades de este sistema la gestión centralizada de caja única es absolutamente recomendable y lo dicen todos los expertos este tipo de sistemas son más seguros cuanto más grandes sean y cuanto más diversificados tengan sus sistemas de generación de ingresos de hecho y lo dije la última vez en este pleno

más amplia que la actual ese sería el futuro que nosotros defendemos en lugar de fraccionar dentro de españa lo que ya tenemos los sistemas de pensiones funcionan mejor

y destinos es la mejor forma de asegurar una institución construida sobre la solidaridad entre generaciones entre territorios entre regímenes y entre diferentes rentas por lo tanto la seguridad social española tiene que configurarse como un sistema de caja única

políticos que son suficientemente importantes sino incluso por cuestiones de propia supervivencia ya que la alternativa a una caja única una caja múltiple en la que cada componente de la misma respondiera de sus propios riesgos lo que sería el primer paso para una segura quiebra de algunas de ellas por eso la quiebra la ruptura de la caja única de la seguridad social no nos interesa absolutamente a nadie no hay que fraccionar el sistema dentro de españa sino incluirlo ampliarlo europa es el sistema público de pensiones una materia de estado elemental fundamental y básica en un estado democrático y de derecho es la base social fundamental que sostiene

es el mantenimiento y el respeto a esa parte importantísima de la sociedad que no solo merece respeto por lo que ha contribuido sino que también demanda dignidad justicia y tranquilidad y que se cuente la verdad que no

que el partido nacionalista vasco que el gobierno vasco mienta al conjunto de la sociedad

nacionalistas una iniciativa y una transaccional perfectamente ilegal y claramente perjudicial para los propios intereses de los ciudadanos vascos en relación a la enmienda de transacción firmada por el grupo popular y grupo socialistas debo decir que me parece que

pero como decía al principio yo creo que es mejor instar al gobierno de españa a garantizar la caja única de la seguridad social a mantener el sistema que tenemos

al gobierno vasco a negociar con el gobierno de españa el traspaso de la gestión porque como digo esa gestión trasladada a euskadi no beneficiaria para nada

más allá de que admito y reconozco que lo que pretendía el partido popular y se propone en esta enmienda de transacción es destapar

no quiere ese traspaso tal y como está recogido en el propio estatuto y la constitución española por lo tanto mantenemos nuestra enmienda que creo que es más directa más clara instar al gobierno de españa a defender un sistema de pensiones público único y unitario para el conjunto del país y a mantener por tanto el sistema

como mejor forma de garantizar la estabilidad y la viabilidad del sistema y con ello la máxima solidaridad e igualdad dentro de españa y el propio bienestar y seguridad

proponemos que el parlamento vasco rechace cualquier pretensión de romper o fragmentar el actual sistema que es lo que propone eh bildu y que es lo que propone el partido nacionalista vasco es por tanto la mejor forma

y al conjunto de los pensionistas españoles hay que defender por lo tanto un sistema de pensiones público universal justo estable y solidario eso es lo que trata de recoger nuestra enmienda de totalidad que evidentemente mantenemos

que no solo se encuentran en una situación de desigualdad para eh bildu es más que eso es una situación

social los datos nos demuestran que seis de cada diez pensionistas vascos y vascas cobran menos de setecientos euros al mes y mientras el estado español

provoca que el poder adquisitivo de los y las pensionistas se mantenga en parámetros irrisorios los gastos que por el contrario tienen que soportar en subsistir

la cesta de la compra o en medicamentos son cada vez mayores por no hablar del gran número de pensionistas que con sus ingresos

porque también se encuentran en una situación económica insostenible ese por tanto no es nuestro modelo

porque lo que sí tenemos claro es que un buen sistema de pensiones

que se empeñe en el reparto de trabajo en unos salarios dignos que aumenten la base de las personas cotizantes y de la distribución de la renta y la riqueza y hoy por hoy las políticas que se están llevando a cabo se alejan de estos propósitos la opción de utilizar los presupuestos públicos como financiación

porque la política fiscal española no da para más beste aldetik atzo bertan

erreserba funtsa agortuko da el problema de fondo por tanto

de pensiones pues todas las reformas que se plantean se hacen desde un enfoque neoliberal

complementando un sistema de pensiones público y privado que no garantiza unas pensiones mínimas dignas

a quienes tienen medios económicos para hacerse su propio plan de pensiones privado no es nuestro modelo ni lo queremos por no hablar de la solidaridad intergeneracional que tantas veces menciona el partido popular

de reserva y como hemos dicho anteriormente es posible que para dos mil dieciocho no quede dinero y los vascos y vascas ya somos solidarios y solidarias

en cuestiones que ni nos repercuten ni nos interesan ni queremos como es lo que ya solidariamente aportamos a los borbones

baina itxaropena ez dugu galtzen aun así pues qué vamos a esperar del gobierno español cuando ayer en lo que se supone que fue uno de los debates

de la legislatura sus líderes políticos no se acuerdan de euskal herria

por eso insistimos en la necesidad de caminar hacia un sistema

nuestro gestionado por nosotras desde el principio

esan duzuna decía usted no hacer demagogia que el lehendakari en la interpelación le decía que no había que hacer demagogia no utilizar el lenguaje del miedo y claro es que qué es demagogia preguntaba usted hacer demagogia es presentar esta iniciativa

ha tenido durante cuatro años mayoría absoluta en el gobierno de españa y como el lehendakari recordó la política que ha seguido es la política del portazo y cada vez que no solo el gobierno vasco se ha presentado en madrid reivindicando y con la agenda vasca

cada vez también que este parlamento vasco en reiteradas ocasiones además ha pedido que se avance en esta materia no ha hecho absolutamente nada el partido popular en el gobierno de españa nunca se ha sentado ni ha dado la posibilidad de poder sentarse en torno a una mesa para avanzar en la negociación de este punto por lo tanto su enmienda en sí es demagogia pura usted hacía referencia en su intervención a la falta de crecimiento de población

y decía que no había que ocultar ese tipo de datos quién ha ocultado ese tipo de datos si el lehendakari en la interpelación que le hacía le decía

hay que tomar medidas la situación exige que cuanto antes se adopten medidas pero no solo en euskadi también le decía

afectan a euskadi y afectan a españa y ahí es cuando le daban los datos que maneiro ha mencionado algunos de ellos por ejemplo aceptan en mayor medida a españa cuando los cotizantes son sesenta y cuatro en euskadi de cien mientras que son cincuenta y siete en españa de cien

que en euskadi pero desde luego nunca jamás creo que habrá oído nunca

a ningún miembro del gobierno ni ningún miembro de nuestro grupo parlamentario ni ningún miembro del pnv pretender ocultar la realidad

sino todo lo contrario alertar de cuál es la situación y que deben abordarse medidas cuanto antes para poder resolver la situación

son mayores que los gastos pues planteando alternativas no solo al gasto

como efectivamente le planteaba el lehendakari en su respuesta planteando alternativas vía impuestos vía modificación de los gastos vía complementando como se ha planteado en otras opciones

como el de los epsv habrá que analizar

y habrá que establecer cuál es el modelo alterando y modificando el ingreso y el gasto en su caso también

se niegan a la transferencia porque es mejor

ustedes se niegan a la transferencia porque es el último bastión que le queda al estado español en euskadi casi el último

por eso se niegan ustedes a la transferencia se refiere a la campaña del gobierno vasco de que el estatuto no se cumple es una realidad como una casa de grande

y usted lo sabe perfectamente lo que pasa que no tiene ningún interés en que se avance en esa materia

del tribunal constitucional usted se queda con algunas sentencias pero se le olvidan otras de todo lo que dicen no está nada

en ese aspecto era nuestra enmienda original mire ese apartado es la interpretación que nosotros hacemos de lo que nos corresponde según

y además todo lo que se plantea son actos de ejecución que están mencionados en la sentencia perfectamente legales y podríamos ir incluso más allá haciendo uso del artículo dieciocho punto dos del estatuto que también podríamos hacer desarrollo legislativo sin entrar en el régimen económico

y podríamos incluso ir más allá es importante que hacer la diferencia y que interioricen la diferencia

que la caja única hasta el tribunal constitucional lo deja bien claro hasta el tribunal constitucional lo deja bien claro no es lo mismo la unidad de caja

respondiendo a nuestro portavoz aitor esteban

que nos dijeran en qué artículo de la constitución se hace referencia a la caja única hasta el tribunal constitucional diferencia los dos aspectos y fíjese que en esta cuestión también el tribunal constitucional ha sacado el famoso cepillo del cepillado

curioso que ustedes el partido popular y el partido socialista ahora firmen una

del sistema público que garantice de pensiones que garantice la dignidad la dignidad de las personas al finalizar su vida laboral ustedes

al margen del pacto de toledo la ley veintitrés barra dos mil trece de veintitrés de diciembre reguladora del factor de sostenibilidad y el índice de revalorización del sistema de pensiones de seguridad social contra el que este parlamento se pronunció

contra esta ley ustedes señores socialistas que usted señora sánchez que se refiere al mayor tajazo a las pensiones

salvo para las contributivas y las mínimas usted señora sánchez

con lo que hacen y con lo que siempre han dicho pues le voy a sacar el programa electoral del partido socialista programa de gobierno

y se lo voy a leer coherentes coherentes

autonómico la gestión del régimen económico de la seguridad social por lo que se debe de prever la creación de una tesorería general del país vasco

en donde al mismo tiempo que unifique los recursos tenga a su cargo los servicios de recaudación y pago esa es la coherencia a la que usted apela por lo visto

que nunca ha habido incumplimiento del estatuto usted que ha firmado con nosotros esto en esta materia

de autonomía para el país vasco cómo entonces pidieron que diera cumplimiento si ya estaba cumplido y si no había incumplimiento

eso de no hay incumplimiento pero pido que haya cumplimiento no entendemos

he visto que tiene mucha curiosidad en la propuesta del partido nacionalista

al respecto porque creo que no la ha entendido en absoluto eskerrik asko gorospe

muchas gracias señora presidenta el partido socialista

pero solo le diré que la última reforma de la ley de pensiones que se aprobó ha permitido que los pensionistas españoles se revaloricen poco

y eso que la inflación era negativa eso que la inflación era negativa y a diferencia de lo que se lo acaban de recordar

con inflación positiva y eso es bajarlas pero bueno yo en cualquier caso como en el fondo y en la transacción

estamos de acuerdo ustedes y nosotros en cómo debe ser el sistema nacional de la seguridad social

la transacción a la que hemos llegado señor maneiro usted me dice que es que su enmienda le insta al gobierno de españa a mantener la caja única oiga y la nuestra al de españa y al vasco a los dos es decir creo que es más completa la nuestra pero bueno

no voy a entrar en eso y bildu nos dice

que su modelo es otro ya lo conocemos nos trajeron aquí al ministro griego

no estamos de acuerdo y no creo que lo estemos nunca

ni en otros muchos y el fondo de reserva se acabará o no

si volvemos a las políticas del partido socialista sí si seguimos aplicando reformas a lo mejor no a lo mejor se vuelve a incrementar el fondo de reserva que por cierto lo creó el partido popular después de llegar en el año noventa y seis al gobierno con la caja a cero

a cero y se creó para cuando en las épocas de crisis y hay paro y no llega la gente pueda recibir las pensiones que tenía y señora gorospe

claro es que nosotros sí pedimos que se cumpla el estatuto es que ustedes dicen pedimos que se cumpla pero no es verdad porque piden otra cosa

tenemos que interpretar la ley y desarrollarla claro y cuando dos no coinciden uno

y dice a ver que nos dice el árbitro y en este caso al árbitro fue el gobierno vasco del partido nacionalista vasco y el árbitro que era el tribunal constitucional

y entonces eso no queremos ya pero es que el árbitro cuando hay interpretaciones distintas que es el que en fin

dijo cómo tenía que ser me dice que

hombre es que en españa hay menos cotizantes claro porque hay más paro porque hay más paro

el ratio personal de personas cuántos cotizantes tenemos por pensionistas es inferior el nuestro en mucho en mucho si somos casi de los peores de españa

hay más cotizantes hoy aquí porcentualmente aquí en españa porque hay menos paro y cuando en españa se reduzca el paro

como estaba y me dice usted que hay que tomar medidas claro que hay que tomar medidas y las venimos pidiendo desde hace cuatro años

qué hemos estado planteando desde hace cuatro años a aquí que seguimos siendo

que el gobierno vasco se tiene que poner las pilas para que se generen puestos de trabajo que vengan empresas que se creen nuevo empleo y que haya más cotizantes

porque eso es lo que salva el sistema que haya más cotizantes que haya más empleados

y todo lo demás es nos dice usted vía impuestos oiga vía impuestos

oiga cuánto pagamos de cupo al año la mitad del déficit de las pensiones del año pasado

de qué estamos hablando o sea de que estamos hablando de lo que financiamos y nos financien vamos a ver si nos dice el partido nacionalista vía impuestos

a ver vía impuestos como compensamos aquí eso dígame

y el planteamiento del partido nacionalista vasco con las que ya hay cuál es que sean obligatorias las nuevas ese sistema nuevo o para compensar

lo juntamos todo con la caja de la seguridad social y los que

pero por favor ya que me dicen los impuestos me puede decir de qué impuestos

en un año para el año pasado para este año serán

de qué impuestos me dice usted que podemos compensar el déficit que tenemos en el país vasco eskerrik asko

gracias presidenta mire señora gorospe he entendido perfectamente y me he leído perfectamente la enmienda

mi grupo parlamentario los socialistas vascos no la compartimos en absoluto y la entendemos perfectamente mire

de investidura celebrado en el congreso de los diputados el portavoz de su partido el señor

que no reinterprete las leyes orgánicas y que respete las competencias

pues bien lo que los socialistas estamos planteando con esta enmienda

en esta materia y que se respeten las competencias que en caso de la gestión del régimen económico de la seguridad social tal cual fue acordada y que los socialistas defendemos lo que establece el estatuto en el artículo dieciocho y en la disposición transitoria quinta no es solo por

que hace compatible la unidad y solidaridad del sistema con su gestión en la comunidad autónoma es la más conveniente para todos los pensionistas

y defendemos que este sistema como indicamos dentro del punto primero de nuestra enmienda y de la enmienda transaccional tiene que ser público lo que me tendrá que explicar

reiteradamente la última vez que yo recuerde el ocho de mayo del dos mil catorce un sistema público universal y digno de pensiones y una lectura estricta del estatuto todas las variantes que ahora nos están planteando con todos sus matices y ustedes lo firmaron señora gorospe

ha aprobado un documento que va más allá ahora y que plantea una seguridad social separada para euskadi y para navarra que no es

alguien que conoce bien el sistema como es la persona que dirigió la secretaría de estado

lo equiparó en su día al cuento de la lechera primero tendrían que explicar cómo se construye esa seguridad social separada de forma unilateral y a las bravas como pretenden los nacionalistas catalanes díganlo lo que realmente quieren pero es que luego todo el planteamiento es pura ficción una sucesión de afirmaciones voluntarias carentes de datos

es público suficiente y regresivo lo de suficiente hay que verlo como ya se ha

porque desde hace diez años el desfase entre las cotizaciones que recauda euskadi y las pensiones que se pagan

y va a incrementarse porque cada vez tenemos menos población nuestros jubilados cobran más y duran más tiempo los discursos pueden engañar los datos no engañan los quinientos treinta y tres mil pensionistas vascos suponen el cinco coma siete por ciento del total pero absorben el siete coma uno por ciento desembolsado por el concepto de la seguridad social

una quinta parte de los presupuestos que habría que destinar a tapar ese agujero y qué recortes se hacen qué servicios habría que recortar para sacarlo

la ruina de las instituciones vascas lo de irregresivo al margen del palabro es de chiste saben perfectamente

a las situaciones cambiantes y nadie puede asegurar y menos hoy que las pensiones existentes

pase lo que pase y lo de público se contradice en su propio documento ya que se dice que la seguridad social

segregada para euskadi y navarra estará compuesta por un sistema público financiado por cotizaciones y tributos y un sistema complementario voluntario y libre es decir

nos están hablando de un sistema mixto semiprivado y nada solidario porque solo va a garantizar

a quienes puedan pagarse un plan de pensiones privado señora blanco dice que no defiende un sistema que se base en parte en el fondo de pensiones pero firma la transaccional que hoy están firmando con el partido nacionalista vasco

donde sí que se está recogiendo esa situación como yo lo he indicado en mi exposición y luego para hacer referencia

ustedes están hablando no solamente de este sistema público propio para euskadi

si no que resulta esencial que el sistema de seguridad social se desarrolle legislativamente ejecute gestione por

antes nosotros evidentemente no estamos de acuerdo con este sistema propio de protección social en euskadi como lo planteen ustedes y lo hemos entendido perfectamente y por eso
vamos a defender y vamos a votar la enmienda transaccional que hemos firmado hoy con el partido popular nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea mixtoa ez du hitzik hartuko

el segundo turno de hablar sobre el programa electoral del

gorospe señora sánchez le animo a que lea usted bien la enmienda de transacción que hemos firmado porque me temo que no lo ha interpretado bien y vamos a la que han firmado ustedes

primer turno no tiene desperdicio porque tener que aguantar que el partido popular reitere su defensa de un sistema de pensiones público que garantice la dignidad de las personas tiene tela hay que tener poca vergüenza para firmar lo que ha firmado

sean lo miserables que son y si a ustedes eso

vivir con unas condiciones mínimas de calidad con unas condiciones dignas

y no voy a seguir comentando lo que viene después porque ya en este primer punto me he atragantado señor damborenea

saben que ni siquiera en lo que concierne a los incrementos anuales de las pensiones se cumple

y vuelvo a recordarle la subida miserable del cero coma veinticinco no

que con eso poco más se llega a tomar un café al mes con la subida una barra de pan

histórico de la reserva de la seguridad social corresponde a la ciudadanía cotizante vasca

y teniendo en cuenta que a día de hoy dicho fondo alcanza la cifra

por lo menos unos dos mil quinientos millónes corresponderían a gestionarlos a la cav

la deuda histórica eso sería un colchón

para abordar esa etapa de transición y además si en su momento el primer gobierno vasco se acogieron a las competencias como educación universidades

más gasto a realizar de lo que se dejaba de pagar por cupo y se salió adelante pues no entendemos en este caso

porqué no señor damborenea se han gastado el cincuenta por ciento del fondo de garantía de pensiones se lo he dicho en el primer turno su sistema está abocado al fracaso y nosotros desde luego no vamos a entrar en culpabilizar en ese bucle que se meten ustedes entre un partido que haya estado en el gobierno de madrid y otro eso da igual en este momento la verdad es que

el grupo que haya estado gobernando en madrid o del color político

porque al final el resultado ha sido el mismo seguramente

que ahora tengamos que jubilarnos a los sesenta y ocho años o a los setenta o vaya usted a saber nos vamos a tener que jubilar la gente de mi quinta por ejemplo

le parece bien y mientras tanto ustedes siguen permitiendo que las personas jóvenes no puedan incorporarse al mercado laboral porque ni hacen políticas para ello

al extranjero evitan así también que las cotizaciones se incrementen

incrementar las pensiones entre un cinco y un quince por ciento a las mujeres

o sea lo que ustedes están proponiendo y lo que ustedes están fomentando es

mujer coneja tenga usted cuatro o cinco hijos porque le vamos a compensar el día en que se jubile

porque ustedes han sido muy buenas ahora si ustedes no han tenido hijos o han tenido uno malas malas se van a quedar con la misma pensión eso es lo que ustedes proponen y no entendemos con qué fin por qué por qué lo hacen por fomentar la natalidad

por los cuidados a los que se han dedicado estas mujeres se están olvidando de tantas y tantas mujeres tantas y tantas mujeres que han tenido que reducir

tantas mujeres que han cotizado muchísimo menos por lo tanto su pensión va a ser mucho más baja porque se han tenido que dedicar a otros cuidados independientemente de que hayan tenido hijos o no por lo tanto

tengo que volver a reiterar una vez más que me alegro del acuerdo que hemos firmado y la verdad si hubieran

señor maneiro en mi primera intervención se me ha olvidado

usted dice que es deficitaria que euskadi es deficitaria desde hace muchos años desde hace cuántos desde el dos mil ocho desde el dos mil nueve sabe durante cuantos años euskadi ha sido

sabe usted cuántos más de cincuenta años más de cincuenta años euskadi siendo contribuyente neto y ahora ustedes nos están diciendo que menos mal

ya van cambiando y veremos a qué llegamos más de cincuenta años siendo contribuyentes netos esa es la realidad señor damborenea me preguntaba cuál era nos preguntaba cuál era el planteamiento del pnv en relación con las

obligatorias no señor damborenea en absoluto el planteamiento es un planteamiento de un sistema complementario

la señora sánchez también se lo ha leído potenciado desde planteamientos sobre todo fiscales

pregunta respuesta para que no diga que no les respondemos pretenden y este es el gran problema el problema es que ustedes pretenden cercenar lo que una ley orgánica establece lo que una ley orgánica pactada lo que una ley orgánica refrendada

y aprobada por el pueblo vasco ustedes pretenden cercenar lo que allí se establece y lo que allí se fija y las competencias que se recogen con leyes ordinarias y los tribunales muchas veces someten sus interpretaciones y consideran ese tipo de leyes y eso

eso sí que no puede ser a un tribunal constitucional que parece una cadena intensiva de cepillado por cierto de muchas cosas también de esta

pretenden señora sánchez

planteamos lo mismo y nosotros lo que hacemos es lo mismo

lo mismo y más detallado para que vayamos avanzando para saber cada uno de qué estamos hablando y lo que estamos haciendo además es denunciar denunciar que treinta y seis años sin seguridad social es un castigo un castigo al que están sometiendo a este pueblo que el debata de inviabilidad del sistema de seguridad social

es una falacia que esto es una cuestión de voluntad política y que ni el partido popular ni el partido socialista

que la sociedad vasca ha interiorizado como dijo el lehendakari que sus pensiones estarán mejor gestionadas y garantizadas en manos del gobierno vasco porque así ha sido y es con el del sistema de salud porque así ha sido y es con el sistema educativo

del modelo vasco de protección social por eso por eso no es ningún mito señor maneiro que aquí

presidente andrea sailburuok isiltasuna mesedez hoy tres de marzo

de especial relevancia en la defensa de los derechos de los trabajadores un día para volver a condenar la masacre que se vivió en esta ciudad pero también para recordar los valores que defendían quienes fueron asesinados como vasco socialista y sindicalista

con este recuerdo con la condena de aquellos asesinatos y con la reivindicación de la solidaridad entre los trabajadores y trabajadoras

esta fecha con el debate de esta moción con la que hablamos también de trabajadores y trabajadoras que vuelven a sumar fuerzas en defensa de sus empleos cuando estos están amenazados mozio hau dakarkigu

mozio honen bitartez konplituarazi lortzen dugun y antes de la defensa de la propuesta socialista una aclaración previa para no pervertir el debate esta iniciativa tiene la intención

todos los esfuerzos públicos todos para conseguir que las empresas en riesgo encuentren caminos para su viabilidad en este esfuerzo público se debe contar con las aportaciones de quienes mejor conocen esas empresas por dentro quienes han contribuido a su funcionamiento

tanto para mantener los empleos como para garantizar susderechos

por tanto no se trata de cuestionar lo que haya hecho el gobierno se trata de aportar mejoras a las iniciativas

ha sido el de acb en sestao y la respuesta ha sido rápida y unánime todos hemos convenido aquí y en otras instituciones en mostrar nuestra solidaridad y apostar por el futuro de la planta el gobierno puso en marcha un poco tarde quizá una mesa de crisis del sector del acero

para trasladar las demandas que compartimos de luchar contra el dumping y abordar una reforma de las tarifas eléctricas y esto nos parece bien pero se puede

en el ejemplo más vivo que tenemos hoy para además de solicitar medidas concretas que pueden y deben realizarse al respecto de la situación de los trabajadores

dar razones que sirvan para alejar los miedos que se manifiestan desde el gobierno en la elaboración de un protocolo de actuación

este parlamento pidió un protocolo especial de acompañamiento y asesoramiento a los representantes de los trabajadores

además de que se garantiza a esos representantes información y cauces para ofrecer sus propuestas de cara a la protección de sus derechos y a participar en planes de viabilidad me permitirán a partir de ahora que les explique el relato de las actuaciones que los socialistas

realizamos desde el mismo día en que se conoció la decisión unilateral

en su acería de sestao primero reunión urgente con las organizaciones sindicales más representativas en la planta para conocer de primera mano sus opiniones sobre la parada planteada por la dirección del grupo análisis sobre la situación de sestao y del conjunto de las plantas ubicadas en euskadi pertenecientes

este lunes en comparecencia del comité de empresa en este parlamento se nos comunicaba

se les fijó a los representantes de los trabajadores ayer día dos de marzo dos reunión con la dirección de la planta de sestao en las instalaciones

solicitó soluciones para los más desfavorecidos con la parada eventuales y personal de contratas y posterior reunión con trabajadores eventuales que quedan fuera

aunque no sea correcto considerar los ere como paraguas tres viaje a bruselas acompañados por las organizaciones sindicales

para primero mantener una reunión con representantes de los grupos más numerosos de la misma el señor tajani ex comisario de industria y eduard martín y asistiendo a la misma el representante permanente del gobierno central

una reunión con los representantes de la comisión allí fuimos testigos de cómo se gestó la acción conjunta de todos los eurodiputados vascos

que además de formular una iniciativa en el parlamento europeo planteando la problemática se han dirigido al ministro soria a los comisarios de mercado interior e industria

frente al acero chino así como la no consideración

mientras no cumpla las condiciones exigibles para ello

que hoy se está reproduciendo literalmente en otras instituciones que marcaba este camino y decíamos que además de nuestra solidaridad y nuestra

todos pedimos al gobierno que se coordinara con todos los agentes sociales e institucionales y si lo repito tal como lo dije en la interpelación es

la declaración institucional e incluimos este texto reseñado a petición de las organizaciones sindicales y los representantes

de este modo lográbamos escaparnos al buenismo de declaraciones solidarias o de compartir preocupaciones con trabajadores y sus representantes que han acordado flexibilidades

para sacar adelante la empresa a pesar de las dificultades que se han conocido desde el inicio de la crisis o lo que acarrea

sin mecanismos de regulación hoy parece aún más pertinente ese protocolo porque hoy son más las empresas con dudas por los vaivenes económicos internacionales y hoy los trabajadores necesitan más

compartidos esto es lo que venimos a reclamar y la razón fundamental

en noviembre de dos mil catorce se trata de coordinar porque si no se hace los problemas que se plantean en estas situaciones conllevan ir dejando muertos que requieren a nuestro entender

respuestas urgentes que no tienen que ver con las acciones a emprender y adoptar ante la lenta burocracia de la comisión europea que desde luego también

esta es la dirección correcta y aquí otra pregunta cómo se han coordinado en el gobierno las actuaciones de la consejería de desarrollo económico y la de empleo y acción social lo digo porque en lo que se desprendía de la respuesta del consejero además de explicar las dificultades de establecer el protocolo no se hablaba de

en más de veinticinco trabajadores eventuales de la planta

porque solo coordinando con los trabajadores podemos dar con las teclas sin

que les puedo convencer que lo adopten uno establecer un seguimiento con los trabajadores y sus representantes de las empresas afectadas

dos coordinar las actuaciones de gobierno en sus diferentes áreas junto a los representantes de los trabajadores de que estos participen de las acciones de gobierno ante las distintas instituciones cuando se den situaciones de crisis en las empresas tres intervenir ante las empresas en las medidas complementarias que se requieran es también

en nuestro periplo conjunto por lo que esta moción viene a sumar a la petición de este protocolo asuntos concretos para la planta de arcelormittal y para las factorías

en la comparecencia que este mismo lunes hemos mantenido en este parlamento en la comisión de desarrollo económico y competitividad esta moción insta al gobierno a que a través de lanbide apruebe planes específicos de formación a los trabajadores

mientras esta se encuentre en la situación de parada indefinida tanto la dirección de la empresa como los trabajadores

de estar en todo momento preparados para una vuelta a la normalidad una vuelta a la producción que requiere lógicamente una formación permanente

por la empresa soluciones a los menos protegidos y que están viendo cómo se extinguen sus contratos soluciones a los eventuales

no paralice la aplicación de los contratos de relevo que ligan a gran parte de los eventuales con su contrato estableciéndose las medidas que posibiliten la no destrucción definitiva de los contratos eventuales y presionando a la dirección de sestao para que adopten medidas paliativas a la rescisión

a los trabajadores de las contratas a otro nivel instamos también al gobierno que explore dentro del campo de los reglamentos comunitarios lo que ya es de aplicación en alguna siderurgia europea como por ejemplo la italiana

de que el país vasco regionalmente pudiese gestionar ayudas que no serían consideradas

basándose en acciones energéticas medioambientales fuimos los primeros en hablar de white certificate y queremos que ustedes lo exploren y lo traigan a euskadi

se sume a las posibilidades de gestión en este campo no necesitan permisos de nadie háganlo cuanto antes porque nuestra siderurgia lo necesita

sino toda nuestra siderurgia el camino no es y ustedes los saben

ante un expediente de regulación de empleo por ello estamos convencidos que esta cámara aprobará la moción que planteamos por unanimidad no cabe otra

a los ciudadanos de la margen izquierda ya de por sí castigados con porcentajes de desempleo inaceptables y también a los miles de trabajadores que hoy viven

los embates de la globalización y de la inacción de la comisión europea ante la misma no quiero olvidarme del capítulo de la responsabilidad de las empresas de aquello que todos asumimos

social de las mismas para este debate tendremos más días pero es deber del gobierno tenerlo en cuenta y exigirle responsabilidad

muchas gracias señora presidenta nosotros teníamos presentada una enmienda de adición

que creo que está recogida en la transaccional que se ha presentado

uno más genérico y otro más concreto uno genérico de empresas genéricas en crisis con problemas en crisis y la forma de actuar

y por lo tanto nos parece correcto lo que se plantea luego está el tema concreto de la acb

y luego hay otro tema derivado de este y de las otras que es la competitividad de las empresas vascas

adición en este punto lo que le insta y lo que instaba al gobierno vasco

para que nuestras empresas sean más competitivas y llevamos así casi toda la legislatura

llevamos así toda la legislatura nosotros tenemos un gobierno vasco y una comunidad autónoma con más competencias que ninguna región de europa

ni del mundo mundial a todos los niveles ni en ingreso

parece mentira que comunidades más o menos limítrofes tengan establecidas

legalmente con el aval de bruselas ayudas o situaciones que las empresas entienden que es mejor para instalarse que por ejemplo aquí cuando estamos hablando en el concreto caso de arcelormittal es evidente que el problema de arcelormittal

de la electricidad es muy importante pero también está claro que no era

cuando se hizo la empresa y por lo visto no era nada importante cuando el gobierno vasco la vendió y de hecho obteniendo beneficios es decir no era ese el problema de los costes de esa empresa

o el problema que tiene esa empresa yo creo que hay que ser claros en esta tribuna hoy

mundial muy fuerte que decide la carga de trabajo a qué empresas va y a partir de determinada carga de trabajo

a partir de determinadas toneladas y a partir de otras ya no es rentable entonces aquí hay una primera medida

que en su momento fue y participó con la bbk de esa empresa es evidente que alguna responsabilidad tiene que tener

y esto de salir diciendo que el problema es el de la luz

pero también tenemos más caro aquí que en asturias por ejemplo y por qué lo tenemos aquí más caro que en asturias

por qué es más caro por decisiones propias se pueden modificar para abaratar esos costes por ejemplo como en asturias

esas son las preguntas que nos tenemos que hacer y esas son las preguntas que el gobierno vasco tendría tendría que responder y eso es lo que nosotros instamos con nuestra enmienda que el gobierno no solo en eltema de la acb sino en el tema de todas las empresas porque además ya llegamos a un acuerdo

que nunca acuerda con el pnv nada me acuerdo que en esta materia se llegó a un acuerdo para rebajar la tarifa en su momento hace dos años o tres años yo de eso sí me acuerdo para rebajarlo al cincuenta por ciento eso que no se acuerda con nadie porque

pero se hizo se hizo la base acordó se hizo y los problemas de la acb son otros

que del gobierno vasco que dice que está buscando un socio

para hacerse cargo de la empresa la he visto en el deia no la he visto en más sitios

pero supongo que siendo el deia será verdad para el caso de que

se vaya o lo cierre o haga algo pero también supongo que para buscar un nuevo socio inversor habrá que hablar con el dueño actual

que nos envíen a la cámara los contratos de deuda para ver si es verdad o no es verdad que había posibilidad de recompra

y sí nos gustaría que el gobierno nos explicará un poco esta situación porque nosotros le vemos al gobierno que se ha reunido antes de ayer con los trabajadores por primera vez y lleva un mes haciendo declaraciones exigiendo a todo el mundo a bruselas lo que tiene que hacer al gobierno de españa lo que tiene que hacer a todo el mundo lo que tiene hacer

ni eso ni eso y por lo tanto nosotros hemos hecho una enmienda

no es el de la acb es el de todas las acerías y si miramos la pérdida de producción de acero en el país vasco en los últimos años pues oiga estamos en la mitad de lo que hacíamos y por lo tanto no es la acb son todas

y por lo tanto habrá que buscar fórmulas que si parecen que existen en otras partes

yo no sé si hay que tomar medidas fiscales

con las empresas para que la empresa nos diga exactamente cuál es su problema espero que no sea el que han decidido

porque si no además estaríamos aquí hablando de la nada a la hora de adoptar medidas o buscar soluciones porque si la decisión es cerrar la planta

en este caso saber de primera mano cuáles son las intenciones de la empresa porque todas las demás medidas que se tomen si no sirven para que no se cierre la planta

quedando muy bien con los trabajadores o con los señores trabajadores como decía en su momento

diciendo cosas que quedan muy bien todos estamos a favor de los trabajadores pero a la hora de la verdad

porque claro es una más es una más de más cargas también para eso y por eso desde hace cuatro años le venimos diciendo a este gobierno que tiene que adoptar medidas

primero que las empresas que tenemos no se vayan y segundo atraer empresas que creen empleo que creen empleo y eso es lo que no está ocurriendo

vamos perdiendo empresas y un año es una y otro año es otra y al año siguiente es otra y eso es lo que no puede ser y eso es lo que un gobierno y más

entiendo yo que debería de ser su preocupación entiendo yo sobre todo si es muy nacionalista y lo que quiere además

aquí todo el mundo entiendo que lo que quiere para que todo el mundo viva mejor oiga

y bueno nosotros como hemos visto que en fin que nuestra enmienda se recoge adecuadamente instándole al gobierno vasco a que se ponga las pilas de una vez y emplee y empiece a adoptar medidas que fomenten la competitividad

es por lo que votaremos a favor eskerrik asko damborenea jauna

ha mencionado también el señor damborenea genérica mientras que la segunda parte hace relación a una cuestión y a una empresa concreta a

más específico la primera parte la parte genérica

y no debería ser necesario por dos razones muy contundentes ambas en primer lugar porque ya este parlamento ha expresado su voluntad sobre esta cuestión sobre la cuestión de la necesidad de la existencia de un protocolo en el acompañamiento a empresas en crisis lo ha hecho en un pleno

precisamente además a iniciativa de mi grupo parlamentario y por tanto no deberíamos vernos hoy aquí abocados y abocadas a exigir que se cumpla lo que ya se ha comprometido

en términos políticos con anterioridad que exista pero es que no solo

por la que no deberíamos estar aquí hoy discutiendo de nuevo esta cuestión es que además es de una lógica tan aplastante es de una sensatez tan absoluta es de una transversalidad ideológica tan amplia

tan de razón si hubiera un contenido ideológico profundo si hubiera razones para una discrepancia

no sé qué diferencias competenciales o ideológicas en torno al eje izquierda o derecha pero es que aquí estamos hablando y ya sé que es un término del que se abusa mucho y del que se hacen incluso bromas en redes sociales pero estamos hablando de sentido común estamos hablando

el primero que acuda sea el gobierno vasco con toda su panoplia de recursos para ponerse a disposición de los trabajadores de esa empresa para asesorarles acompañarles y ayudarles en todo lo posible y aquí ha estado el señor azkue

yo por ahorrarnos tiempo no voy a decir lo que hemos hecho nosotros pero es cierto que hay

que todo un gobierno como el gobierno vasco y que sin embargo sí implementan este tipo de protocolos y somos humildes parlamentarios humildes grupos

muchísimo más limitados y con una legitimidad moral y una capacitación evidentemente mucho más limitada que la que tiene el gobierno vasco no es normal

por unas razones u otras ha estado más o menos donde debía estar en empresas mucho más pequeñas y con currelas que estaban

ahí también hemos estado y hemos estado con muchas de estas empresas y en todas hemos visto una constante que se repetía que es la situación de desesperación de angustia porque se van a la calle

económica estamos viviendo y en ese momento necesitan de forma urgente respuestas a sus preguntas

de mantener abiertas todas las empresas que tienen dificultades porque hay cuestiones que se escapan a la cuestión o al ámbito de la voluntariedad no todo se puede arreglar pero sí se puede exigir que se esté junto a ellos y ellas en esos momentos y no solo para darles una palmada en la espalda o para que sientan el calor

pero también para que se les asesore se les ayude porque son trabajadores y trabajadoras de diferentes sectores que no tienen por qué ser expertos y expertas en economía que no tienen por qué dominar cuestiones como en el caso acb que ya corresponde plenamente al ámbito de la geopolítica

es que no tienen por qué ser ellos y ellas los que pongan sobre la mesa esas respuestas tiene que ser la sociedad

de las opciones que tienen si se van al paro si no se van al paro si hay formación si no hay formación si hay líneas de ayudas si no hay líneas de ayuda si se puede

con la empresa o no todo eso no debería ser necesario estar discutiendo aquí pero bueno reitero esta batería de argumentaciones

el mensaje cala y se pone en marcha lo que decía antes ya está aprobado y además es de puro sentido común

yo he estado escuchando al gobierno vasco en reuniones con empresarios y todo eran parabienes y todo eran ofrecimientos

ese es el trato que tiene el gobierno vasco con los empresarios y en cambio con los trabajadores hay una distancia absoluta una frialdad absoluta se interviene siempre tarde

es que han pasado más de cuarenta días para que el gobierno vasco se dignara a reunirse con el comité de empresa

social y político de este país prácticamente para reunirse con el comité de empresa

y el último de la cola el gobierno vasco que no digo que no haya hecho cosas en otras instancias pero que me parece absolutamente revelador sean los últimos en reunirse y que además hayan tenido que ser los propios trabajadores

para solicitar esta reunión es como decía muy revelador

que hay que dar prioridad a cerrar filas a cerrar filas y a buscar una solución

esta cuestión aquí y someterla a debate me alegro de que una vez que se haya traído y nosotros también hemos intentado

a la hora de enfocar este asunto pero creo que deben resolverse en otro marco y que aquí hay que buscar en la medida de lo posible

siempre bajo los parámetros de que la prioridad absoluta debe ser garantizar la continuidad el futuro de la empresa y de los puestos de trabajo

van a tener un respaldo y es que el gobierno vasco también utiliza la interlocución la capacidad interlocución y la legitimidad política y los recursos

para echar una mano para echar una mano al futuro de la empresa como tal y en esta

abordar problemática específicas como pueden ser eventuales subcontratas e industria auxiliar nosotros también hacíamos una alusión a la margen izquierda en nuestra

esta moción pero evidentemente el horno no está para bollos y la margen izquierda no está para cerrar

que supuso durante mucho tiempo y que todavía está en recorrido judicial

durante mucho tiempo la pervivencia del astillero de la naval vemos la situación en la que está acb vemos que tubos reunidos está también con un ere que es otra de las grandes empresas y vemos que realmente las pocas empresas industriales potentes que quedan en la margen izquierda

complicada y esperamos y luego desarrollaremos porque se me está agotando el tiempo esperamos que haya una política en la cual el gobierno vasco

en permanente contacto con los trabajadores y también con esta cámara no queremos enterarnos por un periódico que se están buscando nuevos inversores

por supuesto que vamos a ser discretos pero no queremos que las cosas se hagan así porque si no se rompe la confianza y esa confianza inicial que decíamos

empezaremos a hacer política y a hacer críticas considerándonos liberados de otros compromisos y como decía antes

con la cuestión eléctrica con la cuestión del dumping

que se encargue de garantizar el futuro de la empresa porque arcelor da la impresión de que no quiere ser ayudado

ser ayudado pero arcelor se está escondiendo no da la cara no propone nada no genera confianza

no sabemos si apuesta por sestao o está preparando su salida por eso hay que exigirle y creo que el gobierno vasco y esta cámara tiene que exigir a arcelor que dé un paso al frente

porque no se puede permitir que siga jugando con el futuro de una fábrica que es evidentemente importantísima desde el punto de vista del empleo para aquellas personas que trabajan en ella

egin ez zela pasan las legislaturas y el estado español no debate en profundidad sobre su modelo productivo ni cuál es su papel

en él podría decir que allá ellos que ellos verán pero esa inexistencia de una política

por parte del estado pues cómo no afecta también a la industria vasca

lo estamos demostrando día sí y día también está siendo una legislatura con bastante actividad parlamentaria dirigida al debate sobre las medidas

comprometidas por lo que debemos de tratar de resolverlos juntos entrando de lleno en la moción presentada en este caso por el partido socialista es una moción a nuestro juicio para entenderla bien que aprovechando el caso de arcelormittal y la planta

en estas últimas semanas somos muchos los agentes los partidos políticos e instituciones que hemos tenido ocasión

y de las propias contratas es de destacar que tanto la dirección como los trabajadores han puesto encima de la mesa los problemas a los que se enfrentan y que la interlocución y posible mediación

hay varios componentes justificados o no que han llevado a la dirección al cierre temporal de la planta

que como decía antes diversos agentes e instituciones estamos intentando solucionar lo que está en nuestras manos a lo que podamos alcanzar y

ayuntamiento de sestao en este caso por ser la institución más cercana a la ubicación

y el gobierno español cada uno a su ritmo europarlamentarios los partidos políticos

siderúrgica sino que el problema afecta a todo un sector

en todas las empresas y el consejero el señor toña ya

respondiendo a la interpelación del partido socialista que tiene que haber una disposición favorable por todas las partes para que el gobierno pueda tratar de mediar y de colaborar en el primer punto que presenta el partido socialista en su moción y que el resto de enmendantes sugieren también una redacción

especial sobre trabajadores de empresas en dificultades que atención incluya información permanente a los representantes de los trabajadores sobre la situación de la

por un lado empresas en dificultades sugerimos que desgraciadamente hay muchas y además con diferentes tipos de dificultades la casuística es muy amplia y es muy variada cómo vamos a obligar a las empresas

si no lo desean hacer el ámbito de la empresa es un ámbito privado y la negociación colectiva y relaciones laborales son ámbitos privativos de las partes empresarial y social la intervención púbica se produce en casos concretos como por ejemplo un expediente de regulación de empleo y no solo está protocolizada

por la legislación correspondiente existen también procedimientos de mediación tendentes a favorecer el diálogo y la comunicación entre las partes incluso procedimientos de arbitraje para la resolución de conflictos

sino que dependen de la voluntad de las partes en la gestión de estos ámbitos privativos de las relaciones laborales por tanto la intervención pública no solo está protocolizada

las instituciones no pueden sustituir ni a la parte empresarial ni a la parte social en materia de información o cualquier aspecto de las relaciones laborales más allá

acuerden en cada uno de los casos solo las empresas que anuncian por ejemplo expedientes de regulación de empleo están obligadas a facilitar datos sobre su situación pero en principio

tiene que ser voluntad de las partes el poder colaborar mediar y aportar soluciones desde el gobierno u otras instituciones y en eso está el gobierno vasco

el gobierno atiende y debe atender caso a caso porque cada caso es un mundo y no deberían plantearlo

a hacer algo que no puede hacer legalmente y segundo porque incluso pudiera ser contraproducente

de esa empresa por lo tanto es tan importante no perdón

en el que hablan de la formación donde ustedes piden planes de formación específicos primero es tan importante incorporar en un plan formativo público

incorporar en un plan formativo público como pueden ser los de lanbide a una persona física

en un expediente de regulación de empleo a una contrata de la planta de

electricista que se ha quedado sin desempleo en una empresa de un taller de solo cinco trabajadores en eso creo que estamos totalmente de acuerdo y que no debería de haber discriminación alguna por lo tanto los planes de empleo deben de ser abiertos

así no específicos para unas personas solas pero es que

a todos los trabajadores que estén en un expediente de regulación de empleo puede crear otro problema a nuestro juicio que señala en la segunda parte que será mientras se articulan además fórmulas de viabilidad que recuperen la actividad

ese ere hasta el treinta y uno de diciembre les vamos a discriminar positivamente frente a otros desempleados que

incluso no están cobrando nada esa discriminación no podemos hacer no podemos hacer

para trabajadores que se encuentran en una situación

están esperando además a que la planta se reabra esa discriminación no puede hacerla

dado que los itinerarios formativos de lanbide son y deben de ser abiertos y debemos trabajar para que todas las personas en situación de paro o expedientes

de los certificados de profesionalidad que pueden ser complementarios a la formación y muy útiles en su desarrollo profesional

enmienda en la que habla de intervenir de manera eficaz con la actuación conjunta entre lanbide y el departamento de educación con el fin de otorgar a los trabajadores el correspondiente

que superen las pruebas del dispositivo de reconocimiento de la competencia porque así se acordó además en la mesa de diálogo

unánime y bueno en nuestro caso nuestra enmienda finaliza con un tercer punto que sí han recogido en su enmienda de transacción y que tiene que ver con la eficiencia energética y con las propuestas y alternativas concretas y responsables a fin

al gobierno del estado como a la comisión europea un compromiso con carácter urgente en este sentido debemos ser conscientes de la respuesta singularizada y particular

cada una de las empresas este gobierno está actuando actúa en cada una de las situaciones en el sentido con la filosofía que se recogió en esa propuesta de resolución que se aprobó en noviembre del año dos mil catorce propuesta de resolución a la que este grupo parlamentario votó en contra por los mismos criterios por las mismas razones que les estoy poniendo hoy aquí delante son muchas las actuaciones desplegadas por parte

empresas a fin de facilitar información sobre posibles actuaciones públicas

es tecnológicamente sostenible tiene una plantilla propia y auxiliar bien formada y debería

antes que después en eso estamos trabajando esta institución y el resto de instituciones que nos acompañan y si esta moción va dirigida

mediación sí si las partes quieren y lo permiten certificaciones de profesionalidad y formación y reivindicación de unas políticas

más homogéneas en la unión europea entre otras cosas las que desde este grupo solicitamos eskerrik asko eskerrik asko corrales andrea

votaré a favor de la transaccional que finalmente se nos ha presentado y firmado

yo creo que hay momentos

que no nos creemos la verdad señora corrales

el compañero de eh bildu a las razones sobre el protocolo no voy a insistir yo creo que es una aplicación exclusivamente de sentido común y lo que he leído y lo que he aportado para que realmente se entienda y se realice ese protocolo es

que no se pueda aceptar en cualquier caso dos cuestiones formación específica ha habido siempre

ha habido siempre en estos sectores y más además cuando están en crisis se ha hablado de lo de ayer yo creo que lo de ayer es un paso de compromiso lo que hizo el candidato a presidente de gobierno

en el día de ayer porque en la investidura hablar de un problema que efectivamente entre el pnv y nosotros lo podemos hablar y lo hemos hablado pero hablar en la investidura de una parte sustancial que es el tema

sino a la siderurgia vasca en su totalidad yo creo que estas cuestiones tenemos que en positivo siempre yo no sé si hay contradicciones hoy se decía en la prensa

se lo he escuchado personalmente he escuchado decir qué fácil lo hace estados unidos poniendo medidas antidumping que puedan llegar a doscientos

y qué difícil es conseguir que en la unión europea

se acate en un planísimo muchísimo menor como dieciséis euros sí hay de todas formas lo que sí estoy de acuerdo que si las noticias que hoy aparecen en la prensa en relación a ampararse en la funcionalidad del gobierno con respecto a los ahorros energéticos sí solicito al partido popular el grupo popular que por favor inste al señor soria a que la funcionalidad no sea un óbice para poder actuar en el rebaje

de las medidas energéticas no estamos ante un problema exclusivamente

exclusivamente español es verdad estamos ante la apuesta seria sobre algo muy muy clave y es la supervivencia o no de parte de la industria importantísima en europa la siderurgia eso es verdad

y por eso se tiene que actuar en la unión europea y la unión europea tiene que adoptar implementar las medidas que el dos mil trece aprobó

y acero no es que no exista nada y ahí es donde debemos empujar y todos a la vez yo creo que la globalización está ahí y que requiere regulación y lo que no podemos

exclusivamente basada en la economía liberal haga pagar todos los esfuerzos a los trabajadores sean chinos o de euskadi

proactiva de ahí de que sea nuestra garantía frente a la globalización pero mientras tanto y mientras tanto que

definámoslo y hagámosla porque no podemos decir y ampararnos en decir que mientras otros no hagan nosotros tampoco sería absurdo yo creo que tenemos que avanzar todos

de protección cada vez mayor a los que están más desprotegidos en esta globalización y es ante el carácter que han adoptado las empresas y ante eso nuevas respuestas señor toña de verdad nuevas respuestas

con los trabajadores de arcelor y con todos los trabajadores

en euskadi estamos convencidos que ustedes también

muchas gracias señora presidenta yo no tengo duda

es rentable y es viable si como dijeron los propios trabajadores son capaces de poner una bovina

más barata de las que se fabrican en alemania por lo tanto el problema

no es ese el problema es evidente que es otro

de que son las empresas las que tienen que adoptar las medidas necesarias y en su caso solicitar a los gobiernos las ayudas necesarias para por ejemplo poder vender en alemania esas bovinas

y señor azkue muy brevemente es decir el señor soria evidentemente está en funciones

que esté y planteé en la unión europea como lo hizo el lunes pasado donde corresponde en el consejo europeo de competitividad que se adopten las medidas antidumping ahora

lo que no me pida es que si estamos hablando aquí de modificar las leyes que regulan el sector eléctrico o las leyes que regulan los impuestos sobre la electricidad pues un gobierno en funciones no tiene capacidad ni iniciativa legislativa ahora bien si usted convence a su partido en madrid de llegar al acuerdo al que tendrían que haber llegado en diciembre

desde enero funcionando todas estas medidas podían estar ya en vigor así que le pido un esfuerzo para que hable con su secretario general

incluidos los trabajadores de la acb eskerrik asko damborenea jauna

señora corrales decía el escritor stendhal que para inspirarse y tomar el pulso y el estilo que quería coger se leía antes de ponerse a escribir unas páginas del código civil pues

digamos el tono frío de su narrativa hiperrealista yo no sé que se ha leído usted pero

de acb no sé si de otras fábricas

desde el punto de vista humano tiene una necesidad de arrope

tiene una necesidad de que alguien le vaya y le asesore de todos los pasos que hay que dar porque se les viene el mundo encima y no se escude en que no es muy preciso el término empresas en dificultades eso se puede arreglar todos sabemos que no estamos hablando de una empresa

o que tenga una huelga no empresas en dificultades cuya viabilidad se vea comprometida y haya evidencias de que esa viabilidad está comprometida

como decía con toda una gama amplia de recursos de lo que dispone para asesorar para estar junto a ellos para darles calor sí pero también para darles soluciones y respuestas concretas a las preguntas que tengan en la medida que eso sea posible no estamos pidiendo lo imposible estamos pidiendo

toda esa responsabilidad pero como decía en la primera intervención doy ya prácticamente

primero porque ya está aprobado por esta cámara y segundo porque es de un sentido común

no me ha dado tiempo a tratar con profundidad en la intervención anterior es fundamental arrancar un compromiso de reapertura de arcelor como mínimo parcial los trabajadores están pidiendo y están poniendo sobre la mesa la posibilidad de que se abra no a tres turnos no a plena producción

la factoría aunque sea de un modo parcial porque eso es poner una especie de pie en la puerta que se quiere cerrar para que esa puerta quede entreabierta para que la factoría siga produciendo para que los trabajadores no se busquen su futuro laboral si les surge otra posibilidad fuera de acb

y carga de trabajo que ya estaba comprometida para que la factoría no pierda su credibilidad

productos que otras factorías no les van a poder suministrar y por tanto creemos que esa es la primera línea de intervención reapertura en el plazo más inmediato posible todas las negociaciones y todas las ofertas y todas las posibilidades que se pongan encima de la mesa de cara a la

con un compromiso explícito con el futuro de la planta de arcelor posibilidades que se exploren y que se deben explorar de conceder algún tipo de beneficio de rebaja fiscal de bonificación por el sistema productivo deben ir como contraprestación a un compromiso expreso con el futuro de la planta no se puede permitir que algunos aprovechen que el pisuerga

tiene que ser una actuación muy específica y muy bien definida para que afecte a quien tiene que afectar ayude a quien tiene que ayudar y como decía tenga como contraprestación

con el futuro de la planta porque la planta de arcelor de sestao tiene dificultades por su propio

pero también tiene ventajas y esas ventajas son las que hay que poner en valor

que socialmente es poco conocido pero es el del acero reciclado ahí están fabricando

en el mercado un acero que ya está usado es cierto que es de alguna medida se puede entender como una planta de reciclaje de acero y también es cierto que sus emisiones y su impacto medioambiental

ahí hay todo un espacio en el cual se puede actuar y bonificar precisamente esas buenas prácticas medioambientales como se proponía en la moción inicial

pero también explorando otro tipo de posibilidades complementarias porque se supone que queremos producir las cosas de una forma más ecológica y sabemos que la industria pesada en general y la del acero en particular

desde un punto de vista medioambiental pero sí es cierto que en una comparativa entre la forma de hacer acero

hay unas inmensas ventajas a favor de acb y eso hay que poner en valor por tanto queremos un compromiso y queremos que se presione a arcelor que no se lave las manos que se presiones a arcelor y como decía antes si arcelor no es capaz de dar un paso al frente que dé un paso al lado

necesita y este país necesita una acb abierta por su impacto sobre empleo sobre el producto interior bruto y porque además es un modelo en un sistema de hacer las cosas en el que creemos y en el que debemos apostar yo algunas veces les he dicho a los trabajadores

no puede ser el hacer lo mismo que hacen los demás o hacemos cosas nuevas o hacemos las cosas de siempre de una forma nueva

de la manera de siempre acb era un ejemplo de cómo en un sector que de por sí

se pueden dar innovaciones tecnológicas que supongan ventajas en este caso del punto de vista medioambiental y también por su versatilidad en otros ámbitos

se nos viene abajo este país va por muy mal camino en el ámbito industrial

moleste ni se enfade conmigo por hacerle esta alusión que le voy a hacer pero

lo que le dijo usted al presidente en funciones

ya está bien con otras palabras de la corrupción además vimos cómo el señor rajoy le correspondió por lo que entendimos que estaban ustedes en muy buena

esa magnífica ocasión que para nosotros usted perdió para haberle entregado al señor rajoy texto de adhesión que hoy ha presentado a esta moción el partido socialista

medidas para bajar y modificar el precio de los impuestos

hecho el otro día y que bueno pues fue una pena que usted perdió ocasión con esa buena sintonía que nos demostraron en este caso en cuanto a la enmienda de transacción que han firmado el

no quiero volver a repetirme pero creemos que lo que es sensato es no protocolizar para todas las empresas sino estudiar

las empresas en malas situaciones

encontramos de sentido común por lo tanto un protocolo general no lo consideramos efectivo tal y como no lo consideramos efectivo y por eso votamos en contra en noviembre del año

para todos soy concejala de empleo y formación en el ayuntamiento de sestao y fomento la formación para todas las empresas por igual para todos los trabajadores y trabajadoras

en un ere sino para todos los trabajadores y trabajadoras

he anotado en positivo lo que dijo ayer el señor sánchez y le agradezco que nos lo reconozca lo único que he dicho es que solo se citó el tema industrial en su intervención sin más he dicho que desde hace años

en esta comunidad en euskadi se habla y se trabaja en materia

que pasa en el estado por lo tanto estamos en sintonía con usted y con su grupo parlamentario pero lo que comentábamos un protocolo legalmente

decide no contar con el propio gobierno y esto también dirigido al señor casanova creemos que

en positivo con ambas partes la parte empresarial y la parte sindical o la parte de los trabajadores o este gobierno no puede intermediar de forma eficaz la formación para todos por igual y

siga siendo su sentidocomún el protocolizar un poco las actuaciones que tiene que realizar el gobierno por igual a todas las empresas pero creemos que lo sensato es que cada una de forma individual aunque sí sería deseoso que vayamos todos en uno en este debate y con el texto que hoy

a las empresas de euskadi porque realmente tenemos que reconocer que hacen verdaderos esfuerzos por hacerse oír por hacerse escuchar y nosotros tenemos que

instituciones por lo tanto nuestro más sincero ánimo a todos los trabajadores y trabajadoras de la planta de arcelor sestao así como a los trabajadores y trabajadoras

de las empresas auxiliares y bueno simplemente desde aquí voy a pedir si nos permiten votar por puntos

y votaremos afirmativamente a los puntos tres y cuatro eskerrik asko eskerrik asko corrales andrea eztabaida amaitu

hay una enmienda de adición primero se vota la de adición y luego la transaccional

la entendemos retirada si estaba subsumida en el texto transaccional retirada la entendeis retirada vale orain

el último estudio específico sobre maltrato entre iguales o acoso escolar en las aulas vascas se presentó

estamos en dos mil dieciséis y se hace preciso

otro estudio específico comparativo que nos permita conocer cuál es la situación real del maltrato entre iguales en nuestras escuelas y cuál ha sido la evolución conocemos efectivamente los datos que nos da

vascos sufren agresiones físicas de forma habitual en los colegios y nos dice que seis de cada cien estudiantes

son víctimas de acoso escolar y el ocho por ciento dicen ser golpeados por compañeros sin duda señorías un drama personal de grandes magnitudes y ante el que hemos de reaccionar

para un niño una niña un joven un adolescente la escuela es casi todo su universo ahí es donde precisamente necesita sentirse incluido comprendido valorado no por ser hijo o hija

por ser ella por su propia fuerza por eso es tan importante que la escuela atienda la educación emocional y la educación intelectual y busque el equilibrio de la persona por eso es tan importante y es preciso que estemos atentos a lo que significa ser víctima

una víctima que hay que educar para que deje de serlo ser victimario

en el sentido de que efectivamente tiene muy baja autoestima y hay que educar para que deje de serlo aquellos testigos silenciosos

de estar callados y aquellas personas que efectivamente

son parte de la comunidad los padres las madres los profesores los psicólogos toda la comunidad importa

preocupados en general por la respuesta no contundente de la interpelación que formulamos el día diecinueve de febrero por parte del gobierno hemos traído aquí esta moción

pidió al gobierno vasco que realizara evaluaciones periódicas investigaciones periódicas sobre el maltrato escolar

las del dos mil nueve y las del dos mil doce no es necesario señorías y en esto coincido con la respuesta dada por el gobierno

año a año pero sí es necesario señorías y esta es la diferencia hacerla de manera periódica y hacer un estudio comparativo específico que nos mida que nos pueda comparar niveles y que nos pueda comparar indicadores por eso

preocupantes que se agrandaban al ser transmitidas por las redes hemos solicitado un estudio

específico de medición de investigación sobre el maltrato escolar en nuestras escuelas y por eso señorías este estudio que queremos mida no solamente

y el índice específico correspondiente a cada uno de los niveles sino también el análisis de la tipología del maltrato en cada uno de los niveles investigados de las circunstancias del entorno de la víctima del victimario la actitud del alumnado ante el maltrato

índice circunstancias conductas más frecuentes y la intervención del centro escolar es decir cuestiones que analizamos en los anteriores estudios y que nos sirven para medir la evolución he de decir señorías

aunque nos ha costado al gobierno y a nosotros nos ha costado la actitud claramente

ha permitido que in extremis serían las nueve de la noche que pudiéramos llegar a un acuerdo

quiero poner esto en valor y sobre todo quiero poner en valor a todas sus señorías que han entendido la importancia del tema y que han permitido
que efectivamente hoy traigamos una proposición no de ley isiltasuna

análisis específico de quinto sexto de primaria cuatro cursos de secundaria que efectivamente pueda ser completado con aquellos datos que se vienen recogiendo en las evaluaciones de diagnóstico la del trece y la del quince y que además se presente ante la comisión de educación

la finalidad no puede ser otra sino la de reforzar e impulsar medidas de prevención y de detección para conseguir la escuela inclusiva

muchas gracias señora presidenta señorías

me da apuro decirlo no vaya a ser que también nos acusen de que tenemos la culpa nosotros

que ya en dos mil siete nosotros trajimos una proposición no de ley a este parlamento como recordaba la señora celaá

trataba de alertar sobre lo que

de poner encima de la mesa una preocupación en relación con el bullying y el acoso escolar en aquella ocasión coincidimos

proposición no de ley con los socialistas y como decía la señora celaá se aprobó efectivamente reclamar al gobierno una serie de acciones en ese sentido en aquella ocasión nos hacíamos eco de diversos informes en concreto el informe

que fue el de mayor trascendencia mediática en aquel momento

a la que nos referimos pero que efectivamente fue seguido de otros por ejemplo de un informe del ararteko que efectivamente hizo

en relación con este asunto que preocupa enormemente a las familias vascas en aquel debate solicitamos al gobierno que elaborara un informe de situación

en nuestra comunidad y que el parlamento vasco fuera informado

algo que desde luego no se ha cumplido en los últimos años desde el dos mil doce

hoy como en aquel momento tenemos nuevos informes el informe

vascos y del conjunto de españa hace referencia

en la que efectivamente volvía a recordar que no solo no se ha mejorado la situación sino que

alumnos vascos sufren agresiones físicas de forma habitual en los colegios el seis por ciento de los alumnos

de los centros educativos vascos son víctimas del bullying y alerta de que efectivamente no estamos hablando de un juego de niños sino que se trata de violencia

necesita y debemos reclamar medidas urgentes para evitar ese sufrimiento de los menores y

secuelas y que incluso en algunos casos puede conducir al suicidio este resultado

de los adolescentes reconoce haber sufrido violencia escolar

la encuesta se realizó el año pasado dos mil quince y casi un cinco por ciento es víctima de insultos de humillaciones a través también de las redes sociales este estudio incluye datos significativos y no es un estudio menor es un estudio en el que han participado

en el caso de euskadi uno dos mil doscientos luego nos puede llevar

probado sobre el que el departamento de educación tiene que efectivamente tomar medidas y adelantarse en el ejercicio de acciones que sean efectivamente efectivas el

a algunos compañeros y dos de cada cien confesó que se ensañó con un menor

también a través las redes sociales lo que se conoce como

debemos con estos datos encima de la mesa como les decía reflexionar sobre la gravedad del problema y la necesidad de poner medios para atajarlo se ha hablado de protocolos efectivamente seguimos necesitando

protocolos que permiten a los centros a actuar de una manera rápido y efectiva pero claro no vale solo

en las manifestaciones o lazos cuando llega el día

o cuando se trata del abuso a menores por parte de profesores cuando tenemos un problema necesitamos que se ataje el problema y que el departamento

lo que nosotros esperamos es que esta enmienda

sirva de manera positiva para que el departamento de educación ponga los medios al alcance de los profesores de los de los centros públicos para que efectivamente se pueda evitar de una manera mucho más eficaz el acoso escolar y combatir

comparto lo que se recoge en esa transaccional y por lo tanto

ez dira haurren arteko jolasak de acuerdo a estudios e investigaciones la mayoría de los malos tratos entre el alumnado problemas de acoso agresiones

en muchos centros escolares y sus observatorios de la convivencia se está trabajando desde los proyectos de coeducación y prevención de la violencia no son uno sino muchos

desde el gobierno se han puesto en marcha en dos mil trece el departamento de educación puso en marcha el plan director para la coeducación y la prevención de la violencia de género en el sistema educativo

centros y garantizar la formación de las personas que forman la comunidad educativa

actualmente hay unos trescientos centros participando los claustros cuentan con la posibilidad de desarrollar un módulo de formación de diez horas en algunos centros ya lo están haciendo y se espera que el curso próximo se haga de forma bastantes masiva

han tenido y tienen la opción de participar en cursos de formación estos centros están desarrollando proyectos de coeducación y prevención de la violencia de género han partido de pequeños diagnósticos y cada uno ha decidido sobre qué aspectos trabajar para que su centro sea cada vez más coeducativo

los centros en próximos cursos tendrán que revisar sus proyectos de convivencia e integrar la perspectiva de género tal y como dice el plan director para la coeducación y la prevención de la violencia de género

como puede ser la competencia para aprender a convivir competencia para aprender a hacer la competencia para aprender a pensar la competencia para hacer por una misma la autonomía personal

pero participando todo el centro no vale únicamente que participe en matemáticas y en lenguaje y no lo haga en ciencias no han de hacerlo todos conjuntamente todos y todas

que los proyectos educativos integrales que incluyen valores ya se vienen implementando mediante las distintas competencias que he citado y se extenderán durante el desarrollo de heziberri dos mil veinte

la administración educativa ha procurado siempre poner a su disposición los necesarios recursos materiales y ayuda así se creó en el curso dos mil cuatro dos mil cinco la guía de actuación en los centros educativos de la comunidad autónoma de euskadi

en los casos en los que se detecte o se tenga conocimiento de una posible situación de acoso escolar una guía que sin duda sirve de gran ayuda al profesorado y equipos directivos

compleja problemática la guía ha sido periódicamente actualizada en dos mil siete y dos mil once para adaptarse a los nuevos tiempos y necesidades en noviembre de dos mil quince el gobierno vasco ha llevado a cabo una nueva actualización para lo que ha tenido en cuenta las sugerencias y aportaciones de los centros de los diversos servicios de la administración educativa y de otras instituciones así como la información derivada de la investigación y los estudios realizados

constituye un elemento esencial ante la máxima tolerancia cero al acoso escolar entre iguales que debe imperar en todos los centros también cabe destacar a nuestro entender el convenio firmado entre el departamento de seguridad y el departamento de educación en dos mil trece

comportamientos incívicos o grupos juveniles organizados y la acogida

de seguimiento del convenio por tanto pues como bien ha dicho la señora ubera durante su intervención este es un problema no solo del ámbito educativo sino que toda la sociedad por tanto entendemos positivo la colaboración entre diferentes departamentos y que cada uno pueda aportar en la medida que le compete

necesarias medidas de inmediato hasta estos días hasta presente

primeramente mediante estudios muestrales en ochenta y cuatro centros de quinto y sexto de educación primaria

segundo tercero y cuarto de educación secundaria obligatoria realizados en los años dos mil cinco dos mil ocho dos mil nueve y dos mil doce

y dos mil quince ambos estudios

no es representativa a nivel de centro o a nivel de modelo educativo y titularidad de centro aunque sí ofrece una visión general

el segundo estudio permite disponer de la evaluación del índice general de maltrato de los tipos de maltrato y de las conductas de maltrato a nivel no solo del conjunto del sistema

esta segunda guía permite identificar qué centros educativos muestran los mayores y menores índices de maltrato entre el dos mil trece y dos mil quince

o ha empeorado y proponer las medidas correctoras necesarias por tanto vemos positivo el acuerdo hoy adoptado entre el grupo socialista eh bildu y nuestro grupo y parece ser que el final será apoyado unánimemente por todos los grupos

todo el esfuerzo que desde el departamento y la comunidad educativa se está haciendo con el fin de eliminar de raíz el acoso escolar

espainiar gobernua ez da gobernu britainiarra el tres de marzo de mil novecientos setenta y seis hace hoy cuarenta años se perpetró

una matanza un día como hoy aquí en gasteiz las calles se tiñeron de sangre las campanas tañeron a muerto

de terrorismo de estado sin embargo sus víctimas no son así consideradas fue un acto de terrorismo de estado sin embargo curiosamente no hay terroristas de estado perseguidos juzgados

se produjo un asesinato con asesinados pero sin asesinos sin embargo aquellos perpetradores eran conocidos o era al menos fácil seguir su pista los policías armados que dispararon más de dos mil balas que dispararon gases lacrimógenos fueron dirigidos por jesús quintana saracibar

y la compañía de guarnición de gasteiz los autores son también aquellos quienes dieron las órdenes

rafael landín órdenes transmitidas por radio dando las órdenes de actuar y en las cuales se puede escuchar a por ellos

gasead la iglesia en esas emisiones de radio también se escucha cómo se les felicitó por el deber cumplido buen servicio hemos contribuido a la paliza más grande de la historia aquí ha habido

palabras que en esas transmisiones reconocían los hechos y que actúan como verdaderos testimonios auto inculpatorios también hubo otros responsables responsables políticos responsables últimos de aquella masacre y también son conocidos tienen nombres fueron rodolfo martín villa ministro de relaciones sindicales y manuel

ministro de gobernación todos ellos toda la cadena de mando toda la escala de responsabilidad desde el primer policía armado

es a día de hoy cuarenta años más tarde absolutamente impune espainiar justizia administrazioak beste alde batera begiratu du denbora

berretsi egiten dugu por eso traemos hoy este debate

en el dos mil seis ha quedado obsoleta y corta

hoy nadie parece dudar de que la justicia española debía investigar perseguir condenar a los infractores por el contrario constatamos que se ha parapetado una y otra vez en la ley de amnistía

para no hacerlo hoy nadie parece dudar de que los hechos constituyen crímenes de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles por el contrario

con más proximidad y con más sentir democrático quien haya actuado hoy nadie parece dudar de que el gobierno español tanto el actual

son sucesores directos de aquel régimen franquista con el cual no se produjo una ruptura y por lo tanto responsables últimos

por el contrario cuarenta años más tarde el gobierno español niega reconocimiento niega sus responsabilidades pero más aún opera otorgando

que aquel otro régimen franquista que sucede y que continúa hoy el gobierno español impide extradiciones y con ello protege a los criminales hoy nadie parece dudar de que esas víctimas tengan derecho al reconocimiento a la reparación

por el contrario estas víctimas han recibido esa reparación en una calidad y en una cantidad muy inferior a otras víctimas hoy nadie parece dudar de que esas ni ninguna otra víctima debieran sufrir la doble victimización que supone

justicia o reparación por el contrario las víctimas del tres de marzo se ven en la obligación de seguir movilizándose se ven en la obligación de seguir peleando para conseguir sus derechos hoy nadie parece dudar de que las instituciones gasteiztarras las alavesas las vascas las europeas

las universales intentan paliar esa situación en la que se encuentran esa diferencia de trato por el contrario creemos

y se debe hacer algo más hoy nadie debería dudar de las recomendaciones internacionales que exigen igualdad de trato a las víctimas que exigen

de leyes de amnistía que establece que delitos de esa humanidad no prescriben y que por lo tanto se deben perseguir sin embargo

el pp se opone a asumir esas recomendaciones internacionales hoy nadie debería dudar pero se duda y es por eso precisamente

queremos pasar de las dudas a las certezas con esta transaccional a la que hemos podido llegar con el pnv y con el psoe queremos dar

declaración pero además con contenidos con un reconocimiento y con una reparación que nos autoimponga deberes una declaración que propone pasos concretos y efectivos a dar camino consideramos que ese es el mejor homenaje que podemos hacer a las víctimas del tres de marzo de aquí de gasteiz

pedro maría martínez ocio josé castillo francisco

hace hoy cuarenta años se produjo en nuestra ciudad una masacre que ocasionó cinco muertes y más de cien heridos cuarenta y dos de ellos de bala los que por edad y compromiso participamos de aquellos hechos

el horror de aquel tres de marzo y la rabia en las manifestaciones de duelo de los días posteriores parte de esa rabia

a los monumentos que recuerdan aquellos hechos queremos reiterar nuestra más firme condena a este tipo de actos fascistas hoy recordamos a pedro

francisco aznar romualdo barroso que fallecieron aquel mismo día

que murieron poco después a causa de las heridas de bala recibidas poco vamos a aportar

en las juntas generales de álava en el ayuntamiento de vitoria en los foros ciudadanos al respecto de lo que aquel día ocurrió o cada uno de los que aquel tres de marzo estuvimos en las manifestaciones de la mañana en la asamblea de san francisco o en sus cercanías tenemos algo que contar

como he dicho antes estos hechos han estado presentes en los debates de las instituciones y en la sociedad vitoriana y alavesa por eso las juntas generales de álava dieron hace años el paso de reconocer a las víctimas y compensarlas el gobierno vasco encargó un dictamen al instituto valentín de foronda

además de recordar la masacre queremos avanzar en ese reconocimiento no puede negarse que se han dado pasos de reconocimiento el decreto ciento siete barra dos mil doce que dictó el anterior gobierno vasco del lehendakari patxi lópez cuya consejera de justicia

fue un hito de reconocimiento reparación rehabilitación e indemnización a las víctimas de aquellos hechos se incluyó como no podía ser de otra manera a las víctimas del tres de marzo en el conjunto de las víctimas de vulneración de derechos humanos

se han abierto otras vías de reconocimiento el mencionado decreto del gobierno vasco o la ley cincuenta y dos barra dos mil siete por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas compensatorias

para poder conocer la verdad y rehabilitar a las víctimas no debemos desdeñar esta vía para el conjunto de víctimas del franquismo hay que recuperar las acciones que se contemplan en esa ley

para que se pueda continuar con las labores de investigación hasta conseguir el conocimiento de la verdad y a continuación abordar la reparación a las víctimas he dicho

porque si bien está vigente durante los años en los que ha gobernado el pp de rajoy se le han negado los mínimos recursos para que pudiera surtir efectos

creemos que hay que avanzar en otra línea como es la vía penal aspecto en el que no se ha hecho el mismo recorrido que en el administrativo en los meses posteriores a los hechos hubo un baile entre juzgados porque parece que

ni la civil querían enredarse en el asunto al final un año después en marzo de mil novecientos setenta y siete un juzgado militar dictaminó que se habían producido homicidios

se llegó a la prescripción hubo años en los que esta vía parecía cerrada el juez garzón en dos mil ocho quiso abrirla para juzgar crímenes franquistas pero todos sabemos cómo acabo con el juez inhabilitado y una sentencia del supremo que aducía a la vigencia de la ley

aquellos delitos que se produjeron durante el franquismo de todas formas

por medio de la interposición de una querella en un juzgado argentino la querella fue aceptada y la jueza maría servini de cubría inició las diligencias este parlamento aprobó

de la comisión de derechos humanos del mismo tuvimos la oportunidad de asistir a la audiencia que la jueza concedió a las víctimas denunciantes entre las que se encontraban

en base a las interpretaciones antes mencionadas ni la justicia española ni el gobierno español han colaborado con esta querella a sus autos últimamente hemos conocido otras interpretaciones sobre la posibilidad de que en españa

a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad durante el franquismo se basan en la convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra

y en las declaraciones y convención de la onu sobre desapariciones forzadas caben dos opciones para abrir procesos judiciales sobre aquellos crímenes una que se considere la normativa sobre justicia universal como de obligado cumplimiento superior a la española y la otra que se reforme la ley de amnistía en base a todas estas razones hemos firmado como ha anunciado el portavoz que me ha precedido en la palabra hemos firmado junto con el grupo nacionalistas vascos y una enmienda transaccional que recoge los aspectos que he mencionado por supuesto que en un día como este

de este parlamento con las víctimas del tres de marzo demanda a la administración de justicia que abandone su inacción y cumpla con la normativa internacional proclama que todas las víctimas deben tener un trato igualitario en el reconocimiento reparación rehabilitación e indemnización por último se insta al gobierno español a que otorgue a las víctimas del tres de marzo el trato que les corresponde y al gobierno vasco

gracias presidenta señorías

saludar a los representantes de la asociación tres de marzo que nos acompañan en este pleno parlamentario en un día como este y lo primero que quiero expresar

con las víctimas del tres de marzo con sus familias nuestro reconocimiento nuestro homenaje y nuestra condena por la brutal operación policial que causó la muerte de cinco trabajadores y heridas a otras muchas personas aquel

invierno de mil novecientos setenta y cinco y también como no puede ser de otra manera

de los que hemos sido testigos y hemos tenido noticias en las últimas horas algo inadmisible y que merece toda la condena y todo el rechazo de la sociedad

hemos visto que ha habido una enmienda de transacción por parte de tres grupos parlamentarios

quitando un punto que ahora me referiré y que en ese sentido pediremos

a parte pero sí que es cierto que la enmienda de transacción vuelvo a decir recoge gran parte de las cuestiones que nosotros habíamos trasladado en nuestra enmienda de totalidad por un lado esa solidad y esa condena como no puede ser de otra manera por los hechos

el recuerdo de nuestras propias declaraciones parlamentarias aquí se ha trabajado también sobre esa cuestión ha habido declaraciones

en una comisión especial que se celebró en este parlamento o sea que en ese sentido también podemos ver que las cuestiones se recogen y desde luego la actuación el uso de nuestras competencias y facultades para desde luego para la reparación

para el homenaje para el reconocimiento de las víctimas en ese sentido por eso se recogen básicamente en la mayoría de los puntos

lo planteado también por nosotros y lo que nosotros entendemos que es de justicia

de todas maneras las denuncias eso la palabra denuncias venía en el texto original de la proposición no de ley

inacción de la justicia no estamos de acuerdo nosotros con ese planteamiento

y ahí tendremos la discrepancia en la iniciativa que ustedes nos plantean

acusar a la administración de justicia de inacción por aplicar la ley

los jueces españoles durante este tiempo han hecho en algunas de las cuestiones

la ley de amnistía y en ese sentido no estamos de acuerdo con

y de hacerle que aplique responsabilidades penales cuando no puede en base a la aplicación de una ley en vigor en españa de una ley además tan importante

a la que ahora me referiré la justicia española desde nuestro punto de vista y desde luego lo defendemos

obstaculizado ningún proceso de investigación ha aplicado la ley en vigor la justicia española no podía establecer responsabilidades penales

se lo impedía y la aplicación de esa ley se lo impide

penal ni puede haber juicio penal por delitos prescritos o amnistiados son otros los instrumentos a utilizar para identificar la verdad histórica

podríamos decir que lamentablemente o no pero en este caso no los judiciales yo creo que ha quedado claro en muchas afirmaciones y en muchos autos judiciales

efectivamente como todo hay una controversia jurídica pero los tribunales son los que

ya sé que a ustedes igual esto les da igual pero la seguridad jurídica

se obtienen de la aplicación de las leyes emanadas de los parlamentos nos guste o no es decir y en ese sentido nosotros entendemos que la ley

es un instrumento jurídico que los jueces han aplicado y la ley de amnistía fue

de la transición democrática española fue la gran noticia política que propiciaron y ensalzaron especialmente personalidades todos conocemos y lo hemos recordado y lo hemos visto políticas

como el propio xabier arzalluz y algún otro txiki benegas es decir

sus afirmaciones en relación con el valor de aquel instrumento jurídico

se ha aplicado por parte de la justicia en este país qué pasa que eso que valió entonces ahora hay que nosotros pensamos que sí vale que sí vale y que sí que sirvió para la reconciliación y para garantizar la no repetición y para consolidar el sistema democrático en la sociedad española nosotros pensamos que sí sirvió pensamos como lo que pensaba pues marcelino camacho que decía que consideraba que la pieza

nacional tenía que ser la amnistía eso decía él cómo podíamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a los otros sino borramos ese pasado de una vez para siempre

la amnistía es una política nacional democrática la única consecuente que puede cerrar este pasado de guerras civiles y de cruzadas no son reflexiones de aquel momento

consideraba y decía públicamente que la amnistía es era el paso previo inexcusable para acceder a una situación democrática

a la solución de una situación difícil en la que de alguna manera hay que cortar con un tajo un nudo gordiano así se refería

y valoraba precisamente esa ley ese momento histórico de la transición española ese primer gran momento de la transición española que marcó todo lo demás

han habido por ambas partes también por el poder y algunos bien tristes y bien alevosos para justificar la necesidad de esa ley de amnistía pero efectivamente eso

ha marcado la actuación de los tribunales pues está claro que no debe valer para que no se investiguen para que no se analicen ahí están estudios

y la condena de la historia también es una condena importante que tenemos que valorar las responsabilidades políticas o las responsabilidades

pues vamos a seguir avanzando lo han hecho institutos históricos y universitarios

trataremos y lo queremos propiciar en definitiva yo les ruego a los proponentes que nos dejen votar

desde luego el primer punto donde se manifiesta la solidaridad a las víctimas del tres de marzo y a sus familiares y la condena de la masacre que ocurrió pues está bien claro que lo hemos manifestado lo defendemos y desde luego

en este caso producidas por agentes del orden público en igualdad respecto a otras víctimas está bien claro que sí nosotros eso lo valoramos y lo defendemos y el parlamento vasco exige al gobierno español que otorgue a las víctimas del tres de marzo el reconocimiento y la reparación que les corresponde por supuesto e insta al gobierno vasco también a que

en función de sus capacidades y sus facultades que continúe materializando ese derecho a las víctimas

discrepamos como ya he explicado del segundo punto que constata la inacción de la administración de justicia y

responsabilidades penales de las que puedan derivarse hemos visto que hay una ley que condiciona esto que esto efectivamente no podemos defenderlo porque nosotros estamos de acuerdo con la aplicación

solicitamos la votación separada del punto segundo muchas gracias eskerrik asko barrio jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria agirre jauna zurea da hitza

bizi izan zuen aquellos sucesos han marcado la vida de gran parte de los ciudadanos y ciudadanas de gasteiz y aún hoy

señorías en mil novecientos setenta y seis no había un régimen democrático el sistema basaba su legitimidad

franquista disponía además de un ordenamiento jurídico que no reconocía a los ciudadanos y ciudadanas

de un auténtico estado democrático el gobierno aquel gobierno aplicaba con rigor métodos represivos frente a los movimientos que luchaban por las libertades

demandas sociales y como controlaba todas las esferas de poder y todos los ámbitos de actividad pública hacía y deshacía

por sus excesos y los de sus agentes y manipulaba además la realidad de lo acontecido construyendo versiones oficiales entrecomillas de los hechos que nada tenían que ver con la realidad

sucedió en vitoria gasteiz aquel tres de marzo a pesar de ello nuestra sociedad es realmente consciente

la versión construida por los responsables de la masacre para eludir sus responsabilidades estudios y dictámenes

por el instituto universitario de historia social valentín de foronda ratifican el convencimiento de que lo que sucedió en vitoria gasteiz fue una injustificada

sic ordenada por un gobierno no democrático

que reivindicaban pacíficamente la mejora

han transcurrido cuarenta años y durante todo este tiempo las víctimas de aquellos sucesos han reclamado de manera incesante

se recogía en aquellos cinco puntos de la declaración institucional de este parlamento

de dos mil seis en ella en esa declaración institucional suscribimos todos los grupos entonces hace diez años en ella se reconocía la condición de víctimas del terrorismo se instaba al gobierno español a que les deparara idéntico tratamiento que a estas y se apoyaba que se dilucidaran

que procedieran pero como ya se ha dicho aquí también

no se ha cumplido son varias por otra parte las iniciativas sociales e institucionales que a lo largo de estos años han intentado restañar aquellas heridas sin embargo la impunidad ha perdurado hasta nuestros días tal y como denunciaba el pasado viernes en la diputación foral de álava nerea la sobrina de pedro mari

de los asesinados sigue por tanto también vigente la pregunta que hacia

quién corto el aliento de aquellos cuerpos tan jóvenes sin otro tesoro que la razón de los que lloran desde esta tribuna mi reconocimiento

que supo expresar con su música el sentimiento de injusticia en el que por cierto algunos insisten cuarenta años después ultrajando con pintura los monolitos levantados en gasteiz y en dulantzi en memoria de las víctimas del tres de marzo

también mi más absoluta condena y mi más absoluto desprecio a los autores de esas pintadas

debatimos una proposición no de ley de euskal herria bildu con quien hemos suscrito una transaccional tanto el partido socialista como nosotros mismos en las que se recoge

una vez más junto a nuestra solidaridad con las víctimas y sus familiares

recogemos también la constatación de la inacción de la administración de justicia en la investigación de estos hechos y el consecuente

penales que procedan se recoge también el emplazamiento al gobierno español a cumplir con el principio de igualdad

a todas las personas que han visto sus derechos humanos conculcados un similar tratamiento y también la petición a nuestro gobierno al gobierno vasco para que continúe impulsandopolíticas de reconocimiento y reparación se ha dicho aquí

el cuatrocientos veintiséis barra dos mil trece relativo a la reparación

la próxima ley que se nos anuncia de represión ilícita o el apoyo explícito que no solo este parlamento sino que también el gobierno vasco hizo a la querella de la juez lo décimos además

señorías termino estamos avanzando en la construcción de una sociedad

una sociedad basada en unas políticas públicas solidas de reconocimiento y de reparación de todas las víctimas una sociedad comprometida por tanto con el rechazo a cualquier vulneración

hoy este parlamento aprobando esta transaccional sin duda alguna va a dar un paso más en este camino eskerrik asko eskerrik asko

dar la bienvenida a la asociación tres de marzo y agradecer su presencia en este debate y en el pleno y en segundo lugar evidentemente mostrar

propias víctimas de la masacre perpetrada por la policía armada el tres de marzo de mil novecientos setenta y seis en esta ciudad

condenar evidentemente los asesinatos cometidos y reivindicar los propósitos y los principios defendidos por aquellos jóvenes trabajadores fundamentalmente defender los derechos laborales de miles de trabajadores y defender también

y las libertades en el conjunto de españa por otro lado cabe decir y reiterar que eh bildu no tiene ninguna legitimidad para

la razón la he explicado en otras ocasiones y la volveré a explicar con toda la calma que ustedes deseen pero también con la mayor de las contundencias quienes colaboraron con eta y siguen a día de hoy sin condenar a eta quienes homenajean a presos etarras excarcelados precisamente por haber sido miembros de la banda terrorista

y quienes tienen las manos manchadas de sangre inocente no pueden defender los derechos de otros inocentes que también fueron asesinados

los derechos humanos no tienen legitimidad para hacerlo

la cara de vergüenza eso solo lo podemos hacer quienes tenemos las manos limpias

algunos de ustedes no las tienen los asesinos y sus cómplices no tienen legitimidad para reivindicarse como defensores de los derechos humanos

la que debatimos ustedes no condenan los crímenes cometidos por eta insisto por lo tanto no tienen legitimidad para plantear una iniciativa

aquellos que dijeron a por ellos o de los que posteriormente dijeron buen trabajo

ustedes han enarbolado en innumerables ocasiones el a por ellos

han también enarbolado el buen trabajo recibiendo con honores a presos etarras excarcelados por lo tanto no sé exactamente a quién se refería

usted ha dicho a por ellos y a planteado

el buen trabajo apuntaré algunos datos primero evidentemente es cierto que el tres de marzo de mil novecientos setenta y seis la policía armada provocó una masacre en vitoria celebración de una asamblea de trabajadores y que los responsables directos nunca han sido juzgados ni los responsables de las unidades que dispararon ni el entonces gobernador ni fraga ni martín villa es decir quienes serían los máximos responsables políticos nunca pasaron por un proceso de investigación y mucho menos por un proceso penal segundo

si admitiéramos que hay delitos que no podrían ser borrados por la ley de amnistía

entonces habría que volver a meter en la cárcel a todos los asesinos etarras que fueron amnistiados y habría que buscar y juzgar a los que se acogieron a esa ley sin pasar por lo tanto las responsabilidades penales son más que cuestionables con una ley de este tipo y si no sirve para dejar sin juzgar a los asesinos del tres de marzo tampoco evidentemente serviría para liberar a los condenados por delitos de sangre

los que no llegaron a ser juzgados tercero en relación a conocer la verdad de los hechos ocurridos se conoce perfectamente qué ocurrió allí y quiénes fueron los responsables directos de la masacre

de foronda donde queda meridianamente claro qué ocurrió aquel día los anteriores

donde se señala a los responsables con nombres y apellidos todos por lo tanto sabemos que los responsables políticos últimos fueron los ministros manuel fraga

y el que dio la orden de desalojo el gobernador civil rafael landín vicuña y otro responsable directo el capitán de la policía armada quien tras los medios antidisturbios ordenó utilizar fuego real jesús quintana saracibar conocemos estos hechos son los datos reales es la historia que evidentemente no en absoluto cuarto sobre el reconocimiento que sin duda merecieron y siguen mereciendo las víctimas de aquella masacre han sido justamente reconocidas

la diputación foral de álava otorgó la medalla de álava a la asociación tres de marzo ha habido múltiples actos de reconocimiento

y pronunciamientos unánimes de este parlamento seguramente no hayan sido suficientes volverán a hacerse es justo y necesario quinto

estas personas están amparadas por la ley de memoria histórica que reconoce como víctimas a las que murieron en defensa de las libertades y los derechos democráticos entre mil novecientos sesenta y ocho

y le reconoce el derecho a ser indemnizados están por lo tanto reconocidos sexto

en la que se reconocían las indemnizaciones anticipadas a las víctimas del tres de marzo recoge las mismas cuantías que la ley de víctimas del terrorismo por decreto de la diputación foral de álava dos mil nueve se dictó el procedimiento para solicitar las indemnizaciones

a pagarlas también el gobierno vasco ha impulsado iniciativas y actuaciones séptimo y en relación al último punto de la iniciativa original se proponer a instar al gobierno a materializar lo que han hecho el gobierno y las justicias

sin embargo ya está hecho como queda explicado en los dos puntos anteriores y se ha producido esa reparación económica y moral y también el ayuntamiento de vitoria y este parlamento han llevado a cabo homenaje hoy mismo se han llevado a cabo

se seguirán produciendo evidentemente estos homenajes que como decía antes son justos y necesarios por tanto las víctimas han recibido diversos y múltiples

y han recibido indemnizaciones seguramente no han sido suficientes pero en fin no parece que la sociedad vasca haya olvidado a las víctimas sino todo lo contrario dicho esto evidentemente volvemos a

contundentemente aquellos hechos y mostramos nuestra solidaridad con familiares y amigos de las víctimas y con las propias víctimas y con todas las personas que durante aquellas jornadas defendieron la dignidad de la sociedad y la libertad

y no solamente eso además condenamos las pintadas que aparecieron esta semana en los monolitos que homenajean a las víctimas del tres de marzo son ataques fascistas a las víctimas de una lucha legítima

que fueron masacradas por un régimen que en aquellos momentos se resquebrajaba y no sabía cómo contener

finalmente la utilización de los símbolos nacionales como la bandera de españa por esos fascistas que solo se representan a sí mismos muchas gracias

nuevamente viene el discurso de condenarlo todo para no responsabilizarse

señor barrio condenan políticamente los hechos de la masacre del tres de marzo aquí en vitoria pero no permite que esa condena sea en la sede en la cual se tienen que emitir este tipo de condenas es decir en sede judicial no permite que sea efectiva la justicia

yo creo que lo ha entendido bien porque es precisamente para eso para lo que traemos esta iniciativa para que se pueda llevar una investigación ordinaria

ordinario y para que de forma ordinaria se puedan depurar responsabilidades que es precisamente el objetivo de esta iniciativa me pregunta si vamos a permitir el voto punto por punto y le digo que no y de voy a dar cuatro razones la primera razón es manuel fraga iribarne

todavía con los cadáveres calientes después de los funerales dijo espero que este triste suceso sirva de gran lección en los próximos meses a todos los españoles una amenaza una advertencia para marcar además

la reforma del régimen franquista y sino aténganse a las consecuencias dos

iñaki oyarzabal dijo el año pasado en una entrevista

en una carga policial dijo que los policías utilizaron armas de fuego para defenderse en un momento en que se vieron acorralados por la multitud cierto también que oyarzabal puntualizó

y decía he defendido que se debería haber actuado contra los responsables policiales y he reclamado una reparación efectiva para las víctimas mi pregunta es cómo se debería de haber actuado mi pregunta es ante quién se debía haber reclamado

me consta también que el señor oyarzabal adoptó algunos compromisos con las víctimas del tres de marzo

en absolutamente nada hace un par de días el señor barrio

las víctimas del tres de marzo y ante ellas aseguró

fue una transición modélica dijo que no todas las víctimas son iguales y yo interpreto que será porque algunas víctimas tal vez

o tal vez mejor muertas que otras dijo que no había un espacio

a preguntas de las propias víctimas no habrá un espacio en ese memorial para reconocer para recordar la masacre más grave que se ha producido en esta ciudad en el tiempo moderno en la historia reciente mire señor barrio no le niego honestidad

cualquier capacidad de empatizar con las víctimas del tres de marzo le niego cualquier atisbo de humanidad por eso

sin ningún tipo de hechos sin ningún tipo de consecuencias nos parecen que no son más que hipocresía y cinismo cuarta razón las esculturas en recuerdo del tres de marzo han sido recientemente atacadas los hechos los ha reivindicado

en lo que a mí respecta estos cuatro expresiones estos cuatro hechos manuel fraga iñaki oyarzabal carmelo barrio

no son sino expresiones de una misma realidad política no son sino expresiones de una
idéntica sensibilidad política es la suya berbotsa isiltasuna no responden sino a su estrategia política berbotsa

mesedez retira lo dicho mesedez

carmelo barrio falange no son si no las piezas del mismo puzle berbotsa hoy no valen condenas

solidaridades huecas berbotsa hoy es momento de asumir responsabilidades

hamar segundo dauzkazu eskerrik asko legebiltzar buru anderea hoy decía no valen

no valen solidaridades vacías si no que es el momento de asumir responsabilidades y pensamos que en esta iniciativa aparece claramente

asumir hoy reclamamos justicia justicia aquella que un obrero escribió en el suelo con sangre de un compañero hace cuarenta años aquí mismo en gasteiz eskerrik asko

creo que va a ser una acción absolutamente baladí porque mi respuesta

al señor barrio verdad pero bueno como quedará en el diario de sesiones

iba a decir que la intervención del partido popular del señor barrio me ha resultado decepcionante pero no es verdad porque uno se decepciona cuando espera alguna cosa y este no era efectivamente el caso este no era no era el caso

del señor barrio del partido popular es decir que el parlamento recuerda la declaración institucional del año hombre es que faltaría más como para olvidarnos de lo que contenía esa declaración que deviene de los sucesos

y el partido popular se queda ahí se queda en el recuerdo bueno a mí ese

de la enmienda de totalidad del partido popular lo único que me demuestra es que ni el señor barrio ni sus compañeros necesitan tomar fosgluten reforzado para reforzar su memoria pero

nada más absolutamente nada más eso sí en su enmienda insta al gobierno vasco a reconocer y a reparar a estas víctimas pero claro y al gobierno suyo y al gobierno de madrid

se le olvida y yo tengo que decir una cosa las víctimas

ni fueron ni son víctimas ocasionadas por las instituciones vascas lo fueron por un gobierno no democrático de acuerdo pero un gobierno de españa y parecería razonable que en primer término fuera precisamente ese gobierno de españa el que resarciera

y el que pidiera perdón a las víctimas del tres de marzo en tercer lugar me parece una absoluta contradicción la del partido popular

fueron capaces de suscribir una declaración institucional en la que en el tercer punto se decía el parlamento vasco reitera su apoyo

de que se haga justicia a las víctimas y se diluciden las responsabilidades que procedan y hoy se apea de lo que había aprobado

total y absoluta aunque como decía al inicio

porque ya hemos visto la posición del partido popular en aquella iniciativa que un compañero de partido hizo en el senado respecto de este mismo tema

o la que se ha planteado todavía no hace mucho en el congreso de los diputados por siete formaciones políticas que ha contado cómo no con el rechazo y yo diría que hasta el desprecio del partido popular alegaba el señor barrio

cualquier cosa en cuanto al enjuiciamiento de los responsables

no voy a contestarle yo le va a contestar

de españa el señor jacinto lara que todavía

me imagino que de esto sabrá bastante más que usted y que yo señor barrio decía que la ley de amnistía no impide investigar y juzgar los hechos del tres de marzo decía la ley de amnistía del setenta y siete

tiene efectos para exonerar de responsabilidad a personas que estén imputadas en procedimientos penales y me parece que esto es bastante relevante porque cuando se trata de crímenes contra la humanidad

y por otro lado también el tema de principio de justicia universal decía el mismo señor lara claro que en el estado español entre la administración

decía textualmente han fabricado un muro que impide en el estado español desde cualquier punto de vista

las responsabilidades además termino señora presidenta yo conocedor en profundidad del derecho pero parecería razonable incluso para los que somos absolutamente legos en esa materia

se aplica sobre hechos ya juzgados sobre sentencias concretas

no ha habido ninguna sentencia que se pueda amnistiar

un tema a debate que creo que merece que hagamos el esfuerzo por procurar el acuerdo y yo diría que incluso

un valor especial mi grupo desde luego cree que este
tema que ahora estamos debatiendo eskerrik asko es uno de ellos la trasnacional
de todo punto de vista razonable y además en poco difiere de aquella declaración de hace diez años en este mismo parlamento y pienso y termino

en este cuarenta aniversario que este parlamento de forma como digo unánime avalara
sus reivindicaciones eskerrik asko en sus manos queda señor barrio eskerrik asko agirre jauna eztabaida amaitu denez sí para pedir de nuevo la votación por puntos

votaremos a favor del conjunto de la proposición de ley

con el segundo punto pero por respeto a las víctimas del tres de marzo muchas

presidenta simplemente por alusiones creo que tengo derecho